en euskadi tras la superación el pasado dieciocho de junio de dos mil veinte

que en euskadi hemos organizado entorno al plan bizi berri el departamento de salud del gobierno vasco ha venido estableciendo las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid hemeretzi así ese mismo día dieciocho de junio de dos mil veinte

si bien sobre la base de su seguimiento y evaluación continua de las mismas con el fin

situación epidemiológica y sanitaria dichas medidas y recomendaciones han venido modificándose en función de la evolución de la situación sanitaria

el objetivo que persiguen las medidas y recomendaciones contenidas en las diferentes órdenes que se han venido dictando por el departamento de salud están dirigidas al control de la transmisión en los ámbitos que actualmente son el origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo y para controlar

y en ese cometido efectivamente los cuerpos y policías de euskadi la ertzaintza y las policías locales en el periodo comprendido entre el dieciocho de junio y ayer quince de octubre

a normas relacionadas con la salud pública de mayor a menor en porcentaje el setenta y cuatro por ciento de ellas

incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla el dieciséis coma cinco por ciento

lonjas juveniles y botellones el tres coma uno por ciento unas quinientos cuatro por incumplimiento del uso de la mascarilla en transportes públicos

y el uno coma ocho por ciento doscientos ochenta y seis en total por incumplimiento

el resto de las infracciones tienen que ver con asuntos menos relevantes pero más allá

los datos que acabo de aportar que no son no pueden ser un fin en sí mismos son útiles y han de ser considerados como una contribución decisiva del departamento de seguridad y del conjunto de los recursos policiales de la comunidad autónoma en la lucha contra la pandemia y resulta

analizar conjuntamente la curva de infracciones y la curva de contagios

pero permite comprobar varias cosas pero sobre todo dos por una parte

que el cumplimiento efectivo de las normas de salud pública que vienen dictándose por parte de la autoridad sanitaria tiene de cara al control efectivo de la pandemia y en segundo lugar esa comparación de ambas curvas de la curva de infracciones y de la curva de contactos permite también intuir

si nadie se hubiera ocupado de hacer efectivo el cumplimiento del conjunto de normas que se han venido dictando desde el área sanitaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos

guztiekin dugun bakanetakoa es una entidad solvente que tiene que seguir dotándose de capital y debe ser un instrumento financiero al servicio de esta sociedad para garantizar la economía

y cuando el río suena agua lleva y a nosotras nos preocupa ese ahora no es necesario por parte del gobierno vasco porque abre la puerta a que en otro momento lo sea

no corresponde al gobierno decidir si es conveniente o no la fusión de kutxabank que en estos momentos es una decisión

y es en base a su información que el gobierno ha respondido kutxabank informa con puntualidad al gobierno su gestión profesional

seria y solvente está reconocida usted misma lo ha dicho nuestro objetivo es que siga manteniendo su capacidad de gestión independencia

en este sentido le recuerdo que es hoy la entidad financiera líder en solvencia y tiene acreditado el mayor dividendo social de todo el estado además tal y como esta semana se ha reflejado en los medios las autoridades europeas no han trasladado la necesidad de analizar el horizonte de la fusión en el caso de kutxabank me permito decir también que

también en nuestro propio entorno no hay un tamaño único óptimo ni un único modelo de negocio viable en el sector un banco cada vez

muchos países en europa cuentan con una extensa red de cajas de ahorro de carácter regional o local altamente competitivas un ejemplo es alemania con más de cuatrocientos entidades los procesos de fusión con los grandes bancos

la mejor opción para la estrategia de futuro es mi opinión kutxabank tiene su propia hoja de ruta que insisto corresponde decidir a la propia entidad financiera eskerrik asko

arriola jauna el informe especial de vivienda social del dos mil veinte del observatorio de vivienda y suelo del actual ministerio de transporte movilidad y agenda que ha cuantificado el parque de viviendas públicas y especialmente las destinadas al alquiler destaca el esfuerzo constante y consistente de euskadi en esta materia tenemos actualmente casi veinticuatro mil viviendas en régimen social en alquiler y solo puede presumir de más parque público que euskadi esto es fruto de dos cuestiones fundamentales primero de la existencia de una ley de vivienda pionera

indudablemente por una innegable voluntad política de este gobierno y especialmente de la consejería de vivienda que usted dirige para centrar

de alquiler resulta que los esfuerzos por impulsar el alquiler en euskadi han sido los más consistentes de todas las comunidades autónomas así en dos mil diecinueve el veinticuatro por ciento del total de las calificaciones provisionales

protegida de alquiler a nivel estatal corresponden a euskadi una de cada cuatro en el período dos mil catorce dos mil diecinueve se ha iniciado la construcción de siete mil ochenta y uno viviendas protegidas de alquiler a nivel estatal y euskadi encabeza el ranking con dos mil trescientos cuarenta en esos cinco

o las cuatrocientos setenta y cuatro por ejemplo de cataluña en los últimos años

de manera sustancial el peso de la nueva promoción de vivienda de protección pública en alquiler con cifras de dos mil diecinueve se puede decir que el veintiuno por ciento de la vivienda protegida

promoción que se eleva al veintinueve por ciento en el caso de la vivienda promovida en euskadi

en el promedio resultante del periodo de dos mil dos al dos mil diecinueve destaca en segundo lugar euskadi con setenta y tres coma ocho euros por habitante muy por encima de la media española cifrada en cuarenta y uno euros por habitante y sin incluir

directo ese esfuerzo se traduce indudablemente en resultados

con alquiler protegido bien por ser parque de alquiler público o por contar también con la ayuda pública en el pago de la renta

son elevados y en la escala la alta protección a nivel europeo está perfectamente referenciada también en lo que se refiere a la política

y su consejería indudablemente hemos sido protagonistas de ese impulso pero creemos también que es el momento de dar un salto cualitativo en ese sentido le formulaba la pregunta sobre las perspectivas y los planes que tienen al respecto de las políticas de alquiler destinadas a personas que no pueden acceder a un mercado

el acceso a la vivienda es un derecho básico y garantizarlo constituye un reto considerable en euskadi y también en toda la union europea nuestro mayor problema sigue siendo

de los países de referencia a pesar del esfuerzo que venimos realizando

un esfuerzo como usted decía reconocido en el último informe especial del ministerio que sitúa a euskadi como la segunda comunidad con mayor número de viviendas sociales en alquiler

en vivienda del conjunto de españa muy por encima del puesto que nos correspondería

este esfuerzo con las limitaciones reseñadas se traduce en resultados como usted también

uno de cada dos hogares en alquiler en euskadi cuenta con algún nivel de protección ya sea porque disponen de una vivienda del parque público de alquiler o por contar con una ayuda pública para el pago del alquiler

en la escala alta europea pero respondiendo a su pregunta en concreto le diré que hoy en día para poder acceder al programa bizigune se establecen unos ingresos mínimos de veintiuno mil euros

y en el caso concreto de las viviendas sociales

lo que viene pasando durante todo este tiempo es que las políticas desarrolladas

se han centrado fundamentalmente en las personas y grupos más desfavorecidos básicamente en

que son el cincuenta y seis por ciento de los inscritos en etxebide

sin embargo ciertamente existe otro importante segmento de la población que también tiene serias dificultades para conseguir una vivienda y me refiero a dieciséis mil ciento ochenta y tres unidades familiares que tienen unos ingresos entre quince mil y treinta y nueve mil euros

por eso consideramos que sin abandonar la atención prioritaria al colectivo de menos recursos pensamos que también hay que atender a este sector social esta convicción está en sintonía con una de las conclusiones del reciente informe del parlamento europeo titulado políticas para asegurar el acceso a una vivienda asequible

a los grupos socialmente menos favorecidos a grupos más amplios de población como por ejemplo las clases medias bajas

satisfechas en el mercado libre en esta línea vamos a seguir apostando

para la emancipación de las personas jóvenes y a impulsar fórmulas de vivienda asequible en alquiler mediante la colaboración público privada

para el desarrollo del cohousing y por otra parte estamos estudiando la posibilidad de que visesa además de promover viviendas sociales que sean

pueda promover de forma sostenible viviendas públicas de vpo a precios asequibles

para movilizar la vivienda vacía combinando también con otras medidas previstas en el reglamento de vivienda deshabitada como es el canon a la vivienda vacía

en relación con un hijo y una madre ambos de origen inmigrante

además de con la imputación por parte de la ertzaintza de varias de tres personas

y por injurias y con varias multas a varios vecinos que también por insultos digamos

fue videograbada entonces la ciudadanía en general pudimos conocer su contenido y cómo se desarrollaron los acontecimientos y el revuelo social de la indignación social que causó

a que se llevara a cabo una investigación interna dentro de la ertzaintza y también nos ha conducido a una resolución del ararteko que se ha producido el diecisiete de septiembre

escasamente un mes en esta resolución el ararteko cuestiona varias cosas de esta actuación policial y en concreto también lo que sí cuestiona es

cuestiona también el modo con el que con carácter general se emplea o se suele emplear a menudo en relación con personas de origen inmigrante y también cuestiona las pesquisas

para esclarecer las circunstancias de esta actuación y en torno a todas estas cuestiones a todos estos cuestionamientos hace

de recomendaciones la pregunta la pregunta que quisiera formular es la siguiente es qué intenciones tiene el departamento

de estas recomendaciones de la resolución de diecisiete de septiembre del ararteko

gustaría preguntar al consejero vicepresidente las multas que se impusieron a los vecinos que videograbaron estas actuaciones se hicieron también

cómo están estas actuaciones si me podría decir algo sobre esta cuestión también eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko

antes de dar respuesta a su pregunta quisiera aportar un dato contextualizador con el fin de poner de manifiesto que el episodio que usted destaca para formular esta pregunta constituye una excepción puntual y no una constante en la actuación que la policía vasca la

durante la época de la pandemia el dato es mire de las miles de actuaciones que se llevaron a cabo

con el estado de alarma ekinbide solamente registró diez quejas por actos relacionados con identificación y detención bien hecha esta precisión me pregunta por las intenciones del departamento de seguridad en relación con el cumplimiento de esta recomendación del diecisiete de septiembre del ararteko la intención del departamento de seguridad en relación con estas

en primer lugar atender a las recomendaciones del ararteko

a las previsiones legales y a las resoluciones judiciales y esta última precisión me parece particularmente pertinente en este caso porque se trata de un asunto que como bien ha puesto de manifiesto usted se encuentra

pendiente por tanto de actuaciones judiciales que puedan ser relevantes en la fijación de los hechos y en la identificación de responsabilidades eskerrik asko eskerrik asko

lo cierto es que habla de una actuación puntual pero ya el ararteko esos informes desde dos mil diez ya nos estaba alertando de una fuerza del uso

de la policía y también de su afectación en especial a personas de origen inmigrante o racializado

amnistía internacional también ha dado cuenta y esta anotación además es algo que se repite en otros informes del ararteko y en otras recomendaciones de años posteriores

de esta situación y ha hecho referencia expresa además al acontecimiento también de san francisco para ilustrar

y además que afecta de manera especial a gente a las personas de origen inmigrante

de actuaciones después de esta misma actuación de actuaciones también

a criterios de razonabilidad que cabe exigir es decir no es un problema puntual yo creo que es un problema que tenemos que reconocer como propio casi estructural y que merece la pena abordar con seriedad eskerrik asko

a la circunstancia de que se trata de un acontecimiento puntual he aportado un dato objetivo no era una percepción personal el hecho de que

no lo convierte en una constante en la actuación de la ertzaintza ni mucho menos

pero como le decía mire el asunto al que se refiere usted está siendo tramitado en este momento por el juzgado de instrucción número tres de bilbao diligencias preliminares cuatrocientos ochenta y uno barra dos mil veinte por un presunto delito de atención

denuncias cruzadas en este sentido y se están analizando en sede judicial exactamente los mismos hechos que habían sido objeto de investigación

y como es habitual en estos casos la incoación de este procedimiento penal ha supuesto la automática paralización de la investigación administrativa interna del departamento de seguridad porque tanto la ley de policía del país vasco como el reglamento de régimen disciplinario de la ertzaintza establecen claramente

hacer suyos inexorablemente todos los hechos declarados probados por una sentencia recaída en el ámbito penal y ello hace que

independiente paralela a la judicial cuando sus conclusiones pueden ser radicalmente distintas a los hechos declarados probados por la sentencia judicial y por tanto

inmenso realizado en el seno de la propia administración pública hay razones por tanto de economía procesal y razones de seguridad jurídica que aconsejan no avanzar en la investigación interna

esa resolución judicial que defina los hechos unos hechos que vinculan

en base a esos hechos declarados probados abrir las instrucciones internas que sean pertinentes

deontológico esta es la actuación que viene llevándose a cabo por parte de la ertzaintza cuando se producen situaciones de este tipo es la más ortodoxa la más correcta y la que

urkullu jaunari señor lehendakari a qué criterio y a qué argumentos obedece que

su ofrecimiento de mano tendida a la oposición eskerrik asko eskerrik asko

zehatz batekin antes de que se cumplan cien días de gobierno la primera quincena de noviembre más concretamente podremos mantener un encuentro de trabajo sobre una base sólida y concreta con los partidos políticos mi criterio es que contar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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea berriro ya estamos viendo cómo las semanas y como los meses

pero su ofrecimiento de diálogo y de mano tendida pues lo hemos visto siguen siendo palabras desde nuestro punto de vista sin contenidos sin sustancia sin fecha para sentarse aunque ahora usted nos lo esté diciendo y le pondré algunos ejemplos dentro de un momento usted no nos ha dado respuesta

que no se tenía que haber hecho en esa fecha se tenía que haber hecho antes porque fue usted precisamente usted

y yo le voy a recordar algunos de esos ofrecimientos primero lo hizo la misma noche electoral dijo que se tenía que reunir

oposición antes de cerrar su acuerdo con el partido socialista había pandemia crisis paro pero usted ya tenía su mayoría y no necesitaba hablar con nadie más lamentablemente

con el partido socialista y sirvió para recordar según usted esa voluntad de llegar a acuerdos y mano tendida con la oposición

otra vez a retórica satisfecha después llegó el debate de investidura y usted mismo repitió ese planteamiento y lo reiteró ante los medios de comunicación diciendo que

un nuevo futuro para euskadi y hemos llegado al día de hoy

sobre la docena larga de asuntos usted los conoce inicio de curso refuerzo de atención primaria fiscalidad ope pendientes problemas en la sanidad

en lo que mi grupo partido popular y ciudadanos le ofrecimos desde el primer momento diálogo y acuerdo y peor que eso en algunos temas como zaldibar la respuesta ha sido la negativa en redondo

para evitar nada más y nada menos que haya una repetición de la catástrofe que nadie quiere ni siquiera a eso se han mostrado dispuestos y la semana pasada es verdad por la prensa

de los nuevos consejeros ante el parlamento entonces dicen cuando finalicen las comparecencias ahí abrirán ustedes una ronda de contactos o sea otra excusa para no dialogar con la oposición en todo este tiempo en realidad permítame el símil taurino es una larga cambiada porque

es que el primer escenario de diálogo será la negociación presupuestaria que prevén ustedes para enero o febrero

seis o siete meses de julio a enero es decir

la octava parte de la legislatura sin sentarse a nada con la oposición señor urkullu la situación no está para pasarnos seis meses sin hablar o tantos meses o más de cien días

ni cien días porque sin duda alguna el problema que tenemos encima de la mesa todos los ciudadanos

están aumentando para el futuro de esta tierra nosotros se lo recuerdo siempre hemos brindado la mano para hablar para sacar

al país de los problemas que está teniendo y lamentablemente pues usted hemos visto que no ha cogido esa mano que le hemos tendido eskerrik asko

de los temas que usted mismo ha citado y que algunos de ellos se han debatido también en esta cámara

espero dut zuen alternatibak eta proposamenak estamos cumpliendo estrictamente señor iturgaiz el compromiso que adquirí ante ustedes en el pleno de investidura

hemos aprobado y remitido a esta cámara el programa de gobierno hemos aprobado y presentado las directrices económico presupuestarias que son la base para

que tiene su calendario su tiempo establecido ayer se celebró el consejo vasco de finanzas el día veintiséis de octubre está anunciada una reunión de trabajo con la presidenta de la comisión europea para conocer en esa fecha en esa fecha de primera mano

y lo estamos contrastando con las instituciones públicas con la mesa de diálogo social con la mesa socioeconómica en un proceso que culminará

este mismo mes y también este mes este mes de octubre tendrá lugar la presentación ante esta cámara de las líneas generales de los departamentos por parte de todas las consejeras

hoy estamos en los cuarenta primeros días de gobierno y antes de que se cumplan cien días de gobierno la primera quincena de noviembre podremos mantener un encuentro como

sobre una base sólida y concreta con los partidos políticos

compartir diagnóstico contrastar propuestas y alcanzar acuerdos en definitiva construir un proceso de colaboración

ante la compleja situación que vivimos hay dos preguntas a las que responder qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo toda la información que estamos elaborando constituye el qué de nuestra propuesta el cómo usted lo conoce bien porque el lema del gobierno es la colaboración y el trabajo compartido en post del bien común este es nuestro criterio y le aseguro que nuestra voluntad es orientar el diálogo a la consecución de acuerdos entiendo que cuento con su disposición

hace apenas quince días desde esta misma tribuna denuncié públicamente la política de puertas giratorias que desde hace años y con total impunidad está ejerciendo este gobierno

en esta ocasión le pregunté al señor lehendakari sin obtener respuesta satisfactoria cuáles habían sido los criterios para nombrar a doña cristina uriarte

en vez de cualquier otro candidato sin que me diera ningún proceso selectivo que velara por la imparcialidad de la decisión y por la optimización de los recursos públicos

que nos aclare cuál es la misión concreta y por lo visto secreta

cuáles son sus funciones y tareas concretas y en qué se basa para justificar una dotación nivel viceconsejera

y lo hago porque desde el decreto de su nombramiento el propio decreto solo indica

en un ejercicio de falta de transparencia y de falta de rigor que llama la atención gracias eskerrik asko gil jauna erantzuteko

primero de educación política lingüística y cultura y segundo después del segundo mandato

educación se los trasladé hace quince días y reitero mi valoración positiva y el reconocimiento a su labor mérito confianza y capacidad le decía hace quince días en todo caso cristina uriarte va a desempeñar las funciones que otorga el ordenamiento en vigor a la comisionada para la ciencia la tecnología y la innovación

ocupa en este momento la plaza que usted cita de forma transitoria hasta que se apruebe el decreto de estructura orgánica tanto el consejo de ciencia tecnología e innovación como la figura de la comisionada que ahora se nombra o se nombrará se creó a través del decreto cuarenta y nueve barra dos mil catorce

más transparencia que la que figura en un decreto imposible eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gil jauna zurea da hitza

forma parte de otra serie de recolocaciones iniciada con la toma de posesión del nuevo gobierno vasco entre ellos está también el nombramiento de jonan fernández y los que iremos conociendo

pagado por todos los vascos de los altos cargos que cesan en su función la agencia de colocación de este gobierno funciona bastante mejor que lanbide qué cree señor urkullu que piensan los ciudadanos vascos este tipo de nombramientos

este tipo de prácticas son un claro síntoma de decadencia y una lacra que debemos hacer desaparecer de una vez por todas necesitamos administración despolitizada un gobierno líder en transparencia un sistema de gestión público basado en la excelencia la imparcialidad la neutralidad política y la eficacia pero sinceramente tengo muchas dudas de que esto sea posible si

legebiltzarburu andrea señor gil que parece que tendremos que llegar a nombrar a los consejeros consejeras a todos los altos cargos de un gobierno sea el gobierno que sea

su criterio en todo caso creo que los altos cargos responden a los partidos políticos que hayan obtenido la mayor confianza de la ciudadanía en este caso creo que

con lo que ha recibido el grupo popular vasco o el grupo vasco popular ciudadanos no obstante no me voy a enredar en lo que es

me referiré a lo que afecta al nombramiento de la comisionada para la ciencia tecnología e innovación

innovación es un órgano de orientación estratégica participación asesoramiento y promoción de la política científica tecnológica

en el ámbito de la comunidad autónoma de euskadi configurado como el instrumento catalizador y coordinador del sistema vasco de ciencia tecnología e innovación

le remito a lo que dice el artículo seis para que tenga usted claro cuáles son las funciones que establece que el lehendakari estará asistido por una persona comisionada

ese mismo artículo establece que corresponde a la persona comisionada impulsar y coordinar el funcionamiento del consejo y en particular

uno elaborar y presentar al consejo la memoria anual de actividades dos realizar el seguimiento de las actuaciones que se ejecuten en el ejercicio de sus funciones tres concertar y firmar los compromisos y convenios necesarios para la realización de sus actuaciones

ejercer la representación institucional de la comunidad autónoma de euskadi por delegación del lehendakari en instituciones órganos u organizaciones públicas y privadas y cinco

propias de la secretaría del consejo junto con el seis que es el resto de las atribuciones que le delegue en el consejo su presidencia estas son las tareas específicas

esta figura de comisionada creada en el año dos mil catorce ha sido ocupada hasta la fecha en funciones por parte del secretario general de presidencia y a partir de este momento

ejercer estas funciones en el marco de una legislatura en la que estos objetivos van a tener un carácter prioritario tal y como recoge nuestro programa de gobierno en todo caso

creo que es facultad del lehendakari nombrar a quienes sean los altos cargos del gobierno en base a su confianza son cargos de confianza

de la ciudadanía vasca no me concentro si

el juego tiene una mala percepción por la ciudadanía vasca casi la mitad de la población considera que el nivel de juego en euskadi su frecuencia y gasto es elevado

los datos indican que los menores y las menores de dieciocho años son los colectivos principales

el juego el ochenta por ciento de la población piensa que el juego no es bueno para la sociedad vasca y que puede provocar graves consecuencias patológicas económicas y sociales que no solo afectan por supuesto a la persona que los padece sino también a su entorno familiar

y para mal el juego es legal en ese sentido el registro de

autodisuasoria y de control y por eso le quería preguntar por su opinión sobre el tema eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor martínez el registro de autoprohibidos como le llama usted y coloquialmente recibe ese nombre constituye un instrumento sin

y limitar los efectos nocivos que la práctica del juego puede producir en determinadas personas muy vulnerables o también para proteger a aquellas personas que pueden padecer o pueden desarrollar ludopatías de algún tipo tan es así y tan está de acuerdo euskadi con ese instrumento que

este registro de hecho opera ya en nuestra comunidad autónoma desde los albores de los años ochenta y en la actualidad después de diferentes regulaciones está contenida su regulación en el artículo dieciocho del reglamento general del juego que es de hace cuatro años tiene plena vigencia pleno desarrollo y está funcionando

transversal pero que afecta especialmente a las clases populares y como los datos indican especialmente a la juventud

individualista que no está ofreciendo alternativas de ocio sanas

para la juventud por eso hemos visto en los últimos años y un problema creciente en nuestras ciudades y nuestros pueblos los locales y casas de apuestas el gobierno vasco cuenta efectivamente

útil y digo esto porque en euskadi según los datos que tenemos

inscrito en este registro novecientos seis están inscritas en el registro estatal es decir que no pueden jugar en euskadi pero tampoco fuera de euskadi cuatrocientos personas están en el registro de euskadi es decir pueden jugar en euskadi pero sí pueden no pueden jugar en euskadi pero pueden jugar en cantabria en burgos o en la rioja

en ambos en este sentido desde el gobierno de españa se propuso la coordinación de estos registros de autoprohibidos el pasado veintiuno de septiembre y el gobierno vasco no respaldó

lo único que suponía es la firma de convenios de colaboración para la interconexión automatizada entre los distintos sistemas de información de los registros que ya existen en el estado y que existen en las comunidades autónomas no entendemos por qué

este principio de acuerdo para posibilitar la coordinación de los registros entre el estado y las comunidades autónomas porque el registro estatal sí que comunica a euskadi y por ello los que se registran en estatal no pueden jugar en euskadi pero los registrados en euskadi al no estar automatizado este sistema

si van el fin de semana por ejemplo a cantabria una de las consecuencias más graves que produce el juego es el surgimiento

como hemos dicho de comportamientos que disminuyen y anulan la percepción del riesgo asociado

al propio juego por eso estas herramientas son las que permiten una herramienta que permite a las personas jugadoras pues autolimitarse en esa capacidad

de nada nos sirve por tanto el registro en euskadi si estamos apuntados aquí podemos ir a otra comunidad autónoma cercana y podemos jugar o estas personas

del estado y diría que más allá en el conjunto de la unión europea para que desde la voluntariedad y el acuerdo pero con coordinación para disminuir el riesgo de las personas con problemas

problemas serios de juego creo que es un tema sencillo dentro de la enorme complejidad que tiene este tema del juego

con voluntad de cooperación y de coordinación con el resto de las comunidades autónomas eskerrik asko martínez jauna

el registro con el resto de los registros del estado en esta misma materia está expresamente prevista en el reglamento

habla de convenios para articular la comunicación de datos y habla de interconexiones de registros estamos absolutamente de acuerdo

de coordinación de transmisión de datos de interoperabilidad entre registros autonómicos

a estos instrumentos que como he hecho en la primera parte de mi intervención son decisivos efectivamente para limitar algunos efectos nocivos y para proteger a determinadas personas

el actual director general de ordenación del juego su compañero mikel arana y antiguo parlamentario vasco efectivamente propuso un planteamiento de coordinación el gobierno vasco no se opuso en absoluto a avanzar hacia esa coordinación lo que no veo claro exactamente es cuál era el procedimiento e instrumentos que se pretendía articular para hacer efectiva esa coordinación

que se modificó el reglamento del órgano para que pudiera estar presente el ministro porque hasta entonces el ministro no solía participar en ese foro

el respeto a las comunidades autónomas va de suyo pero cuando se trata de una iniciativa que procede del gobierno central nunca va de suyo el respeto a las competencias autonómicas hay que comprobarlo efectivamente hay que contrastarlo con el contenido real de las propuestas que se articulan

con las medidas técnicas estamos de acuerdo con las medidas normativas

y cómo se formulan el gobierno vasco en ese foro no es que se opusiera a la adopción de la medida

una abstención que lógicamente era una medida de cautela perfectamente explicada por el director de juego y espectáculos en el seno del órgano cuando adelantó que sin poner ninguna objeción al fondo y al planteamiento

lo que queríamos conocer es con mucho más detalle qué era exactamente lo que se planteaba y en qué términos porque le puedo asegurar que en los últimos tiempos la tecnificación

porque los centralizadores penitentes han descubierto que lo que el mundo analógico no permitía el digital sí que lo permite y ancha es castilla empiezan a invadir terrenos autonómicos vamos a verlo de hecho la colaboración ya está en marcha los elementos técnicos de nuestro registro lo tienen ya

en cuatro meses a elaborar una propuesta concreta vamos a verlo desde la mejor voluntad de cooperación en bien
del instrumento que es efectivo para los efectos de gobierno vasco eskerrik asko erkoreka jauna

enpleguarentzako ere desde que usted fue nombrada consejera señora mendia ha dado muchos titulares y ha manifestado su compromiso con la creación del empleo de calidad

que estábamos de acuerdo pero una va analizando lo que dicen los diferentes miembros de este gobierno lo que dice el lehendakari analiza su acuerdo de gobierno y el plan el programa de reactivación que recientemente nos han presentado o el vídeo resumen de su comparecencia aquí en

y no sé si esto del empleo de calidad no es un poco como esa intención que manifestamos muchas personas a principios de año de ir

el empleo y varios compromisos uno de ellos es el mejorar la calidad del empleo bajando a lo

diren adierazleak ere badiren enpleguaren kalitatearen inguruan y esto ya lo vivimos la anterior legislatura señora mendia y los resultados los conocimos

en los datos pero solo voy a dar uno que proporcionaba la fundación foessa hace aproximadamente un año y que es más que relevante la situación que estamos viviendo

pero la tasa de vulnerabilidad en el empleo se situaba en el diecinueve coma cinco y creciendo gure iritziz orain arteko enplegu politiken porrotaren adierazle

consejero de empleo hace ya algunos años escribió un interesantísimo artículo hace unos meses que se titulaba

hablaba de lo aprendido en la crisis del dos mil ocho de cómo jamás volvimos a la posición inicial de cómo las personas más vulnerables perdieron y siguen perdiendo más y lo volvemos a ver ahora habla del panorama que se nos presenta del sufrimiento que llegará

cero para los y las ciudadanas y los gobiernos y se pregunta reconstrucción volver a la situación anterior no

a la situación anterior la nueva normalidad es algo más que dos metros de distancia y una mascarilla

una nueva forma de afrontar lo que verdaderamente es importante eta euskal herria bilduko

eraldaketa y porque tengo la convicción de que esta cámara comparte este reto y comparte que este eje el de crear empleo y de calidad debe ser transversal debe atravesar todas las políticas del gobierno de forma

hasta europa si compartimos esto tenemos ya un buen punto

primero el análisis debe estar ajustado a la realidad y si hacemos un análisis riguroso tendríamos que ver en qué punto estábamos cuando nos estalló a todos esta pandemia la tasa de paro estaba por debajo del diez por ciento como nos habíamos comprometido el refuerzo de la inspección laboral regularizó dieciocho mil trescientos contratos fraudulentos en cuatro años

preventiva y de formación de los delegados de prevención laboral en las empresas los acuerdos de la mesa de diálogo social han permitido extender los planes de igualdad

porque recuperamos la estabilidad política y el acuerdo entre diferentes que favorecen la actividad económica y el empleo esos son los instrumentos para el empleo de calidad porque el gobierno no es el principal generador de empleo el gobierno crea las condiciones para que las empresas generen ese empleo y establece

esta era la realidad no la descripción casi apocalíptica que se nos ha señalado en ocasiones en esta cámara se estaban haciendo las cosas bien íbamos en la buena dirección y eso hay que saber reconocerlo luego vino la pandemia y esta nos devolvió a la casilla de salida y sí

las teníamos y las seguimos teniendo y me lo han oído decir y lo voy a repetir una vez más este departamento que dirijo no va a ocultar nunca la realidad por dura que sea

de que todo lo que se ha hecho se ha hecho mal estaremos defraudando los esfuerzos realizados por los agentes sociales y económicos durante mucho tiempo y la realidad es incuestionable

en desempleo mil seiscientos noventa y dos menos que en agosto en años anteriores y posteriores a la crisis en septiembre

en años de crisis aumentaba el paro de manera considerable el dato de este mes se asemejaría a datos de épocas de crecimiento de la economía pero hay treinta y uno mil ciento veinticuatro parados más que en septiembre de dos mil diecinueve

el cincuenta y cuatro coma cincuenta y nueve de las personas paradas son mujeres y aumenta el paro de larga duración y ya la mitad de los parados setenta y tres mil quinientos sesenta y seis son de larga duración

un ocho coma noventa y cinco por ciento entre los menores de veinticuatro años y ha subido un ochenta y tres coma veintidós por ciento en un año y en cuanto a la temporalidad crece

por ciento inferior a septiembre del año pasado y los contratos a tiempo parcial son el treinta y siete coma ochenta y nueve y en las mujeres el cincuenta y dos por ciento y en cuanto a la seguridad social hay novecientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cinco afiliados

el crecimiento es superior a septiembre precedentes con crisis o sin crisis

afiliaciones y como ve señora kortajarena no escondo nada no exhibo unas cosas y tapo otras para disimular eso no va conmigo y ya se lo dije hace dos semanas y hace dos días en esta misma cámara

realista hace unos meses en la diputación permanente todos compartíamos una preocupación sobre los efectos económicos y laborales de la pandemia

excepcional sobre todo porque la inmensa mayoría fueron pactados

pronto nos preguntamos si esos empleos realmente se salvarían y ya tenemos las respuestas en euskadi un ochenta y cuatro por ciento de los trabajadores afectados se han reincorporado

si lo conseguimos a pesar del inmenso latigazo del covid

del empleo que pudo haber desaparecido y que no lo ha hecho y no lo ha hecho gracias a la negociación colectiva y al diálogo social porque efectivamente la mesa del diálogo social

un trabajo decente que es aquel que garantiza ingresos dignos en condiciones dignas para poder tener proyectos de vida dignos y en ese foro está otra de las

buscando el acuerdo por encima de las diferencias es una apuesta nítida del anterior y del actual gobierno pero este departamento como ya tuve ocasión de trasladar personalmente a todos los agentes no va a desperdiciar ni una sola aportación que vaya en esa línea

porque otra herramienta imprescindible para potenciar la calidad en el empleo está directamente en nuestras manos en las del gobierno y en las de este parlamento la generación de confianza la serenidad la apuesta por el diálogo saber escuchar y tener disposición al acuerdo porque la apuesta por la estabilidad y el entendimiento entre diferentes

fue un factor esencial para que en la pasada legislatura comenzáramos a corregir tendencias por tanto insistiremos en esas cosas que han funcionado y cambiaremos aquellas

creo además que todos sin excepción hemos compartido la necesidad de que lanbide sea un instrumento realmente útil en la intermediación y eso todavía no se ha conseguido

se le han visto las limitaciones y también en el desarrollo de la ley lanbide ha ido acumulando otras obligaciones

a su objetivo principal su tarea de ofrecer la formación más adecuada y ya he anunciado a esta cámara la intención de analizar con detenimiento la situación de lanbide y vamos a tener que mejorar también mucho la transferencia de datos entre las distintas administraciones para dedicar el menor tiempo y los menores recursos

como si no valiera nada todo lo realizado hasta este momento creo que es una obligación política reconocer aquello que merece la pena preservar y reconocer aquello que se debe mejorar se esté en el gobierno o se esté en la oposición eso hay que reconocerlo siempre

a las empresas y a todos los actores que intervienen en el ámbito económico y laboral que sus esfuerzos del pasado no tienen recorrido futuro que han perdido el tiempo

el esfuerzo ha sido grande ha sido colaborativo y está mereciendo la pena y este es el mejor acicate para mí y para mi departamento y también para el conjunto del gobierno vasco

con el gobierno de españa y también con este parlamento para conseguir sacar este país adelante con todos esos actores vamos a diseñar la estrategia vasca de empleo

la participación de todos los agentes que tengan algo que aportar y la visión de país una estrategia de gobierno en la que se impliquen todos los recursos de todas las instituciones con ellos y con innovación con diálogo y con igualdad así es como pensamos afrontar

legebiltzarburu andrea bueno un nuevo ejercicio de la doctrina del paréntesis no de qué bien iban las cosas

nosotros no podemos compartir y no compartimos y ya lo habíamos trasladado antes de la covid y lo trasladamos también después el principio de realidad nos lo dan los datos usted ha mencionado algunos

maraña de datos pero yo creo que

los últimos tiempos hemos conocido datos más que elocuentes la encuesta de pobreza

reflejaba un cambio en las tendencias y nos llevaba a situaciones bastante complicadas incluso

de los datos de pobreza y desigualdades sociales nunca antes

señora mendia y también hablaba la encuesta que hizo fue esa sobre las trescientos cuarenta mil personas que aun teniendo empleo

de total incertidumbre sin ningún tipo de colchón

si las cosas se torcían y vaya si se nos han torcido

que le preocupaban esas experiencias vitales que estaban detrás de las cifras y esto es lo que hay detrás de las cifras una realidad que como decía fue esa

puede quebrarse en su base y eso es lo que a nosotras verdaderamente nos preocupa porque estamos aquí para plantear un futuro que se establezca en otras

ese es el principio de realidad no se trata ni de hacer catastrofismo ni de hacer autocomplacencia se trata de hablar de las experiencias vitales que se están dando

y de ver cómo podemos construir un futuro en otras condiciones para esas personas

cuando hablamos de políticas públicas no estamos hablando de promover cualquier cosa

es promover políticas que establezcan condiciones para desarrollar proyectos de vida de felicidad y de dignidad eso es lo que a nosotras nos interesa y por eso traemos hoy esta interpelación

este gobierno tiene en la creación del empleo de calidad un eje transversal que atraviesa las políticas

del gobierno yo diría que de todos y los instrumentos que utiliza el gobierno son la inversión que ya se ha decidido

con el resto de instituciones a través de la innovación porque estamos en un momento

preguntas nuevas respuestas nuevas igualdad

entre jóvenes y mayores para acceder a un empleo de calidad diálogo social y concertación de las políticas públicas de empleo

porque no hay empleo decente si no hay salud ni garantías para los trabajadores y trabajadoras refuerzo de la inspección laboral para seguir combatiendo el fraude laboral

para que haga de lanbide un instrumento útil para la formación y la inserción laboral de los trabajadores una nueva estrategia de empleo dos mil treinta con una mirada

y con una visión de país y en ella van a participar todos los agentes sociales y económicos y también los institucionales y la colaboración institucional para evitar solapamientos e ineficacia y también

que esa es una inversión de país y que tantas veces se nos olvida a veces porque los gobiernos no crean empleo le decía antes sino las condiciones para hacerlo posible y para ello nos hace falta serenidad y hoy euskadi se presenta como un territorio propicio

que son el primer paso para crear empleo y eso es así porque llevamos unos años en los que el gobierno vasco está centrado en lo importante en el día a día

en su vida y necesitan confianza y nos gustaría también contar con todos para favorecer entre todos ese escenario de estabilidad y de tranquilidad y miramos a nuestro entorno y vemos que se olvida lo importante que estamos en una crisis más incierta que ninguna otra que hayamos vivido antes y que no es el momento tampoco de hacer campañas ni eslóganes fáciles a veces estas cuestiones porque la pandemia nos ha cambiado todo y no puede ser que sigamos haciendo las cosas como antes y en eso lo comparto con usted yo les hablo de innovar de nuevas fórmulas para buscar ese empleo de calidad y creo también que hay que innovar en política y no dejarse arrastrar por inercias la oposición también debo decirle

la oposición ni cuando hay mayorías absolutas ni cuando no la oposición puede influir en las políticas públicas que haga el gobierno debe controlar al ejecutivo

eh bildu puede aportar a la hoja de ruta que ya ha decidido el gobierno vasco el programa de gobierno seguro que desde su grupo pueden aportar no pedimos contratos de adhesión a esa hoja de ruta pedimos asumir la realidad que vivimos y comprometerse con el país y con su futuro y en el parlamento vasco

por cambiar determinados marcos jurídicos que permitan terminar con la temporalidad la precariedad y todas estas cosas que me alegro mucho que ustedes hayan descubierto después de tantos años

los escaños y una socialista descubre que los gobiernos no crean empleo gaur gestampek egin nahi duen

argazki batzuk ez dituzu ondo ikusiko baina lehendakari inaugura la planta de matricería de gestamp en méjico

el mejor exponente del camino que debe recorrer la economía vasca y un ejemplo en los procesos de internacionalización esaten digute eta hau oso ohikoa da autogintzaren munduan enpresa

es una ayuda para fortalecer a la empresa matriz también en el propio territorio

no es un proceso sano de internalización sino es un proceso claro de deslocalización va a trasladar la producción a otras plantas para buscar un mayor abaratamiento de los costes y eso es algo que este país no puede permitir

que exigiera responsabilidades a las empresas en estos casos pero su gobierno los partidos que sustentan a su gobierno se negaron a admitirla

nosotros tenemos claro que este gobierno tiene que tener toda la capacidad de presión encima de la mesa y tiene que cuestionar todos y cada uno de los convenios ayudas y relaciones que tiene con gestamp si esta empresa sigue empeñada en mandar a la calle a doscientos treinta trabajadores

cientos de millónes y siendo un grupo absolutamente solvente y rentable se lo exigimos a gestamp y se lo pedimos a su gobierno y desde luego adquirimos el compromiso como eh bildu que los veinte días que nos quedan porque es una cuenta atrás antes de que finalice

lo que esté en nuestra mano para cuestionar todas y cada una de las ayudas que ha recibido gestamp en el pasado que está recibiendo en el presente y que pueda recibir en el futuro
si no da marcha atrás en esta decisión eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

muchas gracias señora presidenta señores miembros del gobierno

señor azpiazu señorías bueno señor azpiazu la interpelación

ha leído con antelación y entiendo que tiene también ya una respuesta más o menos

creo que era necesario plantear una interpelación en este sentido para que el gobierno pudiese aclarar pronto esta cuestión aunque es cierto que tiene usted ya

el me imagino que estaba esperando la reunión del consejo vasco de finanzas para tener ya las previsiones

y presentar en la comisión de economía su equipo su gobierno

su plan etcétera su plan de gobierno etcétera lo que pasa es que las claro

la economía lo cierto es que va siempre por delante la actualidad también y en ese sentido

tiene su origen pues en una serie de declaraciones que en realidad tiene su origen en un informe mal leído por parte en mi opinión del gobierno central

relativa al tema de la educación concertada

de aumentar la recaudación para alimentar el presupuesto público y por tanto sus cargas asumiendo no un incremento sino

la educación pública concertada así como la sanidad

así como la sanidad privada en este caso bien a mí esto es una cosa que

tipo globo sonda dieron lugar a una serie de bueno declaraciones también cruzadas usted ha dicho varias veces que no es momento de subir impuestos

y en eso puede contar con nuestro apoyo pero sí que es cierto que el gobierno central de quien es competencia el iva efectivamente el iva que es un impuesto que aunque está su regulación sujeta al derecho de la unión europea

los márgenes poder asumirlo hasta un veinticinco por ciento esperemos que no lo haga está en el veintiuno ahora mismo el máximo

lo que opera bueno usted que preside también o que está en la comisión del consejo vasco de finanzas pues tiene que haber una coordinación con las entidades recaudatorias todo esto

y sobre todo que también preocupa especialmente por la situación y por lo que implica la sanidad pública y privada en euskadi

tiene que ser lo más parecido a ser el doctor no porque todos los departamentos cuando

y usted tendrá que usted será el señor no el de la varita que no que no

vaya por delante tengo un reconocimiento personal y tengo una buena opinión

una persona muy bien formada así como su viceconsejero señor hernando y

en que su departamento pues lleve a cabo las políticas que nosotros también creemos que son muy necesarias habrá oportunidad por tanto como digo de discutir estas cuestiones en la comisión de economía que me toca a mí en este caso bueno presidir

que estamos esperando con mucho interés personalmente y que

estamos en ello y antes de plantearle directamente la interpelación sí que me gustaría compartir unas cuestiones que aunque evidentemente volveremos a y volverán a surgir en esta cámara a lo largo de esta legislatura porque

la economía esencialmente lo que va a depender del resto de políticas públicas evidentemente pero me gustaría

de datos situaciones de perspectiva macroeconómica el nacional global y local

que han facilitado a los grupos sobre el gobierno el programa de gobierno he leído con mucho interés los tres principios la estructura la verdad aquí se nota que

los responsables de organizar proyectos y demás con los compromisos no sé qué los indicadores los responsables tienen ahí el principio segundo reactivar la economía y el empleo que ahí esperan además llegar a situar la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento felipe gonzález creo que fue el

no le fue muy bien eh pero bueno hay margen de maniobra para situar la tasa de desempleo un porcentaje es verdad que es menos impactante luego que una cantidad pero en fin

evidentemente es la actividad económica de las empresas me preocupaba una cosa en el programa simplemente se lo apunto aquí ya lo discutiremos más adelante pero me preocupaba el aspecto relativo a que

o sea asume atraer inversiones fortalecer el autogobierno económico eso sí el ciento cincuenta que para mí es el más importante gestionar los recursos públicos de manera responsable

ahí se atisban una serie de cuestiones por ejemplo que yo creo que va a ser el eje fundamental y por eso esta interpelación para que tengamos tiempo de mirarlo con calma el programa marco de carácter interdepartamental que aunque aparece asignado a lehendakaritza espero que lo lleve

a todos los departamentos evidentemente está asignado formalmente a trabajo y empleo

que su departamento pues tenga algo muy importante que decir y luego la colaboración estrecha con el gobierno español en la materialización

es una cosa que me parece interesante porque cuestiones económicas yo creo que la colaboración tanto con el gobierno nacional como la unión europea es muy importante

la ha metido ha conseguido su equipo meterla ahí y muchas excepciones pero claro proceder a una revisión de la fiscalidad aquí cuando se habla de proceder a una revisión de la fiscalidad nunca es para rebajarla siempre es para subirla entonces

un anuncio que ciertamente me preocupa y me gustaría que aliviara mi preocupación

la situación económica de euskadi también me preocupa un poco la diferencia de los datos

de las magnitudes con las que ha trabajado su gobierno a diferencia de los indicadores de referencia que su gobierno utiliza y luego los de la eref en reciente informe de octubre que me imagino que habrá leído con lupa ustedes plantean y basan su presupuesto van a basar las previsiones y por tanto imagino que el presupuesto

no le deja ni el cuatro entre el tres coma cuatro y el tres coma nueve por ciento es verdad que dice sin incorporar el plan europeo

con el plan europeo pues a ver y entiendo que me dirá no hombre estos serán proyectos tractores que a su vez atraerán más inversiones etcétera bueno habrá que verlo pero hombre yo creo que cinco puntos es ambicioso en este caso creo que usted

los presupuestos son más bien objetivos o deseos a largo plazo pero bueno yo creo que también esa diferencia que creo que la eref les ha pedido qué datos o qué metodologías han utilizado ustedes para ese cálculo

de prácticamente cinco puntos entre lo que ustedes esperan crecer que crezcamos y lo que la eref ha planteado en cuanto al empleo

pues plantea que el gobierno vasco tiene unas previsiones dicen muy optimistas en el lenguaje diplomático de los funcionarios de la eref siete coma nueve por ciento de crecimiento del empleo hablo de dos mil veintiuno todos son datos de dos mil veintiuno como usted bien ha avisado

o sea un ocho por ciento décimos aquí o dicen ustedes que vamos a crecer

que en esto la verdad es que suele acertar bastante ayer fue la reunión del consejo vasco de finanzas que todos esperábamos en este caso me congratulan sus declaraciones bastante más prudentes que las de los tres diputados generales que

la caída es importante en la recaudación yo creo que eso es importante tenerlo

claro esto cuando hay una diferencia entre lo que uno quiere gastar y lo que uno va a ingresar pocas soluciones hay o subes impuestos o deuda ya anunció usted la emisión de un paquete de mil cuatrocientos millónes de deuda es verdad que hay margen la deuda para mí está para los momentos coyunturales no tanto para

algo sistémico en este sentido el aumento

insisto que es algo que me preocupa por muchas razones por la estructura que esto tiene en nuestra comunidad la mayoría de los centros educativos son de iniciativa social no tienen ánimo de lucro

en mi opinión muy importantes además de que estas empresas también crean empleo y también contribuyen al desarrollo de la economía usted lo ha dicho seguramente tendrá oportunidad de repetirlo

y aquí es la interpelación y con esto acabo cuál es la posición de su departamento entorno a estas informaciones relativas a la eventual el aumento de la regulación

como presidente de la comisión de economía hacienda y presupuestos estoy seguro de que nuestro trabajo y colaboración va a ser fructífera en dicha comisión zorionak por ello

lo vamos a hablar el miércoles en la comisión con lo cual yo creo que porque son temas que

bastante más detalladas y lo haremos allí hoy me gustaría hablar más del contenido de su interpelación estrictamente que creo que tiene

no estrictamente nos corresponda en esta cámara tomar decisiones al respecto

en primer lugar porque es un tema en principio hipotético y especulativo para una interpelación en esta cámara no entiendo su inquietud en relación a la posible eliminación

en la sanidad y en la educación privadas y esa preocupación que la comparto plenamente con usted por lo tanto en ese sentido poco podríamos debatir

para que esta cuestión se debata en esa cámara que es donde tienen competencia

pero si me pregunta incluso más como ciudadano que como consejero propiamente porque insisto esta cámara no tiene esa capacidad

ni este parlamento ni las juntas generales de los territorios históricos

en virtud del concierto económico por lo tanto a sabiendas de que poco más que tratar de persuadir al gobierno del señor sánchez

a la educación ni a la sanidad privadas podemos hacer pero trataré de ofrecerle nuestra posición política al respecto en más de una ocasión recientemente cuando me han preguntado sobre la fiscalidad y sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal y usted lo ha dicho hoy

y he querido hacerlo con cierta contundencia que no es el momento para subir los impuestos ninguno

ni otros no es el momento estamos sufriendo una dura crisis sanitaria emocional y económica y tenemos que salir de ella cuanto antes para ello es preciso impulsar las políticas públicas y especialmente las más afectadas como la salud y la educación

y educación públicas como las concertadas y privadas la salud y la educación son prioridades a las que no podemos renunciar muy al contrario las tenemos que apoyar e impulsar sin restricciones la colaboración de todos y de todas es imprescindible para salir

creo que este es el mensaje más importante que me gustaría trasladarle en estos momentos una subida de impuestos iría en sentido contrario a lo que la política económica hoy necesita restringiría la demanda y retrasaría el crecimiento económico

recuperar el empleo y reducir las desigualdades hoy el gasto público financiado con deuda es una de las pocas estrategias de política económica de las que disponemos

en momentos de necesidad creo que en estos momentos en esto señor

coincidir y no es poco en todo caso señor gordillo por lo que he podido saber en relación a las retenciones del gobierno para

esta cuestión parece más un globo sonda para conocer la reacción de los agentes económicos

sociales y de las empresas afectadas que una voluntad firme del gobierno

si el señor sánchez tiene un consenso suficiente incluso dentro de su propio gobierno de todas formas sí quiero decirle que representantes cualificados del mundo educativo privado me han trasladado su gran preocupación por esta cuestión por la eventual aprobación de esta medida insisto preocupación que comparto con ellos

así que al menos esta interpelación puede servirnos para manifestar nítidamente nuestra contraria posición a que pueda adoptarse esta medida efectivamente varios medios de comunicación publicaron recientemente

de proponer la eliminación de la exención de iva a la educación y a la sanidad privada y de acuerdo a varias declaraciones de la ministra

no son más que documentos de trabajo y al menos hasta ahora no hay una propuesta fiscal en firme que puedan comunicar por lo tanto habrá que esperar

y la misma se produce en el sentido que usted señala una propuesta en firme o un anteproyecto de ley o cualquier comunicación oficial dentro del ámbito de la coordinación

y conocer bien si de verdad existen los términos de la propuesta porque realmente una propuesta de esta índole afectaría afectaría a euskadi y mucho todo

como todos saben el impuestos sobre el valor añadido es un impuesto armonizado que

unión europea donde la capacidad normativa de los estados se limita a determinados aspectos expresamente previstos en la regulación comunitaria en concreto en lo que a determinados bienes y servicios sanitarios y educativos se refiere cuestión objeto de esta interpelación la directiva

por una entidad de derecho público estarán exentos del impuesto y permite además otorgar esta exención a la educación y a la sanidad privada bajo algunos supuestos en el caso de los servicios de sanidad existiría la posibilidad de que se grabaran a un tipo reducido sin embargo los servicios educativos no se encuentran entre los bienes y servicios susceptibles de grabarse a un tipo reducido por lo que

la exención no podrían grabarse más que al veintiuno por ciento

en el estado tanto la sanidad como la educación privada han estado exentas sin apenas modificaciones relevantes desde su aprobación de acuerdo al informe de los beneficios fiscales elaborado por la airef que usted ha hecho referencia

en la sanidad privada todos los países todos los países de la unión

aplican la exención en el ámbito de la educación salvo alguna excepción concreta como guarderías o universidad privada

aplican la exención entre tanto entrando en nuestro tejido

que no es otro que el de euskadi y con respecto a la competencia de las instituciones vascas sobre la regulación

y como le decía la comunidad autónoma del país vasco no tiene competencia normativa en este impuesto

expresamente previstos por la regulación comunitaria y en consecuencia las diputaciones forales deberán adaptar la normativa foral de cada uno

en el congreso de los diputados y todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo veintiséis de la ley doce barra dos mil dos de veintitrés de mayo por la que se aprueba el concierto económico con la comunidad autónoma del país vasco que señala que el impuesto sobre el valor añadido es un tributo concertado que se rige por las mismas normas sustantivas

a excepción de los modelos y plazos de ingreso y la recaudación corresponderá a las diputaciones forales dependiendo del lugar del domicilio fiscal de si la cuantía

excedió o no los diez millónes de euros y si se operó exclusivamente en territorio foral o no dicho esto y asumiendo

a la que alude y respecto a la posición del departamento en la eliminación de la exención

nunca se puede valorar de una forma además aislada ni mediante una propuesta que no haya sido suficientemente debatida ante las diferentes instituciones afectadas porque el impacto de una medida de estas características no puede ser únicamente analizado desde el posible impacto por ejemplo en las familias

ha de tenerse en consideración que en caso de eliminarse la exención las entidades

no era deducible que incrementaba el coste del servicio sanitario o educativo

siempre debiera analizarse el posible impacto en las familias o la viabilidad de las empresas que prestan estos servicios sanitarios o educativos desde una perspectiva completa

muchas gracias señor de verdad

pedro maría le agradezco mucho sus aclaraciones y sobre todo el que marque la posición política del gobierno vasco sobre esta cuestión en su departamento porque insisto como usted ha dicho también

y también a personas muy comprometidas con y altos responsables de instituciones también educativas y sanitarias en la comunidad del país vasco

de la coalición es un tema que ciertamente preocupa y también trasladamos ahí las iniciativas

preocupaba bastante y era el propósito de esta interpelación evidentemente luego aparte de la comparecencia que hará usted en la comisión y luego lo que trabajaremos porque me da la sensación de que de aquí a febrero

y así lo haremos además de buena gana tendremos oportunidad de analizar estas cuestiones con mucho más detenimiento pero sí que es cierto que

y sobre todo esa petición de posicionamiento del gobierno que insisto compartimos no es

la solución subir impuestos en nuestra opinión puede ser

el tema de recurrir a la deuda tampoco y se lo digo aquí casi forzado a que diga estas declaraciones que esperaba por dónde iban a ir

en la elaboración de los presupuestos y va a oír bastantes peticiones de ir a lo fácil porque cuando hay este tipo de situaciones

que es aumentar la deuda y no realizar las reformas que siempre son necesarias por eso

de hablar de esto con calma yo creo que es muy conveniente que se utilicen además esos fondos europeos de los que ya se ha hablado en esta cámara que por cierto se hablaba de que se iban a negociar o que se iban a elegir de manera consensuada aquí ha habido grupos que eso no lo tenían muy claro pero bueno esos proyectos europeos ciertamente

la estructura de la administración ciertas estructuras ciertos aspectos de nuestra economía que la hagan más competitiva y sobre todo que la hagan una economía innovadora y una economía que cree empleos porque vuelvo a insistir

por eso hay algunas ideas que le apuntaremos y por cierto con el

gobierno que imagino que estarán también ahí marcándoles en temas de gasto y demás

que hizo ese gobierno en su día que era el informe sobre solapamientos en el seno de la comunidad autónoma del país vasco un informe que cuando se cambión de gobierno desapareció en los servidores

y que hablaba hombre de los solapamientos que había en la comunidad autónoma

se podría ahorrar entre trescientos sesenta y hasta cuatrocientos millónes de euros al año que son insisto

para sanidad para servicios públicos le apunto simplemente estas cuestiones que tendremos oportunidad de discutir

pero y con esto ya quiero terminar sí le avanzo que lo que me gustaría sobre todo es un en temas económicos una discusión

en objetivos y en indicadores que sean siempre claros y presupuestos que no solamente

a los objetivos y conforme a las previsiones de crecimiento que entiendo que está usted ahora mismo trabajando en eso sino sobre todo también en cuanto a la ejecución es verdad que la ejecución de los presupuestos en la comunidad autónoma imagino que ese es el margen de maniobra con el que usted siempre cuenta

es decir yo creo que lo importante de los presupuestos que es una herramienta

políticas sociales el resto pero tiene que ser una herramienta creíble y no estaría más que además en la comisión además de hacer presupuesto y además de que se apruebe luego el presupuesto

ver cómo ha sido la ejecución del presupuesto y analizar posibles elementos de mejora me quedo con su declaración y va a tener todo nuestro apoyo en ese aspecto relativo

y espero que quizá en otros temas muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

me parece muy bien que haya puesto todos estos debates porque de estas cuestiones vamos a hablar largo y tendido las veces que quiera luego en comisión o donde sea

hay que hablar yo creo que esto nos va a permitir a todos avanzar al menos unificar las posiciones

del impacto en las familias en relación ya al tema de la interpelación estrictamente es absolutamente necesario valorar

así como el incremento de gasto público que se podría producir por el potencial aumento de la demanda de la sanidad y educación pública incluso habría que revisar la provisión pública de algunos servicios sanitarios y de educación para que en caso de aprobarse la

de la exención exista opción de acudir al sector público al sistema público por lo tanto no podemos obviar que una medida de estas características impactaría de manera importante también en las políticas propias del gobierno vasco como consecuencia y contestando de nuevo a su pregunta no vemos en la actualidad un momento

que a diario se producen en el ámbito de la sanidad o en la educación

básicos ya habrá tiempo señor gordillo cuando pase la pandemia y esta crisis económica

y decidir qué parte del coste de la crisis debemos afrontar a corto plazo los que estamos hoy viviendo y trabajando aquí en euskadi y qué parte la van a

que hoy estamos asumiendo ese es un debate imprescindible que habrá que hacerlo cuando el panorama mejore pero es un debate que hoy no toca en todo caso señor gordillo le agradezco de nuevo su interpelación y la oportunidad de compartir una posición común en relación al iva

zurea da hitza buenos días gracias

cada cinco años vemos la misma situación en los medios de comunicación el gobierno vasco por medio de etxebide anuncia a los inquilinos de las viviendas de sagastialde propiedad de este organismo que su contrato es improrrogable y que deben abandonar las viviendas estos recurren y solicitan ser reubicados en otras viviendas y la respuesta de la administración

dando soluciones temporales a la vista de esta situación recurrente solicitamos al señor consejero de vivienda la respuesta a la siguiente pregunta qué valoración hace su departamento

gracias señora presidenta señora larrea

utiliza el término de vivienda para referirse a los alojamientos dotacionales de sagastialde en hernani y habla de desalojo

cada cinco años empezando por el final difícilmente puede afirmarse que la situación es recurrente

por una simple razón la adjudicación inicial se produjo en mayo de dos mil quince de modo que ahora es la primera ocasión

y es que como sabrá los alojamientos dotacionales no se consideran vivienda a efectos legales ni tienen la vocación de acoger de forma permanente a las personas residentes

su artículo veintitrés se trata de una solución habitacional para dar respuesta de forma transitoria y temporal y utiliza hasta tres veces este término

y personas que tienen necesidades especiales todos los

es temporal así se comunicó con claridad tanto en el contrato como en la orden en la que se abrió la convocatoria

dotacionales tendrá carácter temporal en ningún caso se prorrogará ni renovará la cesión una vez transcurrido el quinto año desde la misma

la razón es que pasados estos cinco años otras personas demandantes puedan acceder a vivir en estos alojamientos en las mismas condiciones

señor arriola en sagastialde no ha pasado hace cinco años pero es que este tipo de situaciones cuando ustedes hablan de habitaciones o de

es de darles vivienda o darles una solución habitacional a personas que tienen dificultades y esa dificultad

por lo tanto yo lo que quiero decirle es que el problema no es

existente en el país vasco no se aborda de manera integral el gobierno vasco y antes he escuchado en su intervención que ahora ya

de alquiler de las viviendas que promociona el gobierno vasco son de alquiler debían de ser el cien por ciento porque saben lo que pasa que han hecho ustedes durante muchísimos años y me alegra que hayan venido a esta idea es que

porque lo que hacía el gobierno vasco era sorteos para la venta de viviendas a un precio más asequible para que los jóvenes pudiéramos acceder a ellos pero resulta que nuestras vidas

esto cambia porque resulta que los jóvenes ya ni siquiera pueden acceder a la adquisición de esas viviendas y lo que necesitan son viviendas de alquiler

con las políticas de alquiler social que lleva este gobierno durante bastante tiempo en san sebastián en guipúzcoa tenemos inscritos en las listas de etxebide más de nueve mil personas para alquiler social

de alquiler social tenemos en san sebastián novecientos dieciséis es que ni un diez por ciento esas nueve mil personas acabarán yendo al mercado y quizás no tengan los recursos suficientes para tener una vivienda digna en las condiciones en las que ellos lo necesitan por lo tanto

y deben de reforzar los esfuerzos en este asunto eskerrik asko larrea andrea

señora larrea efectivamente las políticas de vivienda que tiene que impulsar el gobierno y que impulsamos

ofrecer en la medida de nuestras capacidades soluciones a las personas que tienen dificultades para acceder a la vivienda en concreto

tengo que decirle que en el mes de marzo desde la delegación de gipuzkoa se le comunicó a estas personas

que y la aplicación del decreto ley covid diecinueve de medidas urgente en materia de vivienda se les prorrogaba automáticamente el contrato por seis meses

si reunían las condiciones y también que se inscribieran

como antigüedad el tiempo que han estado ocupando el alojamiento dotacional

la pasada semana se les informó a las personas afectadas que cuentan una prórroga adicional por otro lado

personas que reúnen las condiciones del derecho subjetivo se les ha informado

y al ayuntamiento de hernani con el que estamos trabajando estrechamente se le ha indicado que valore a través de sus servicios sociales si alguna otra persona queda en situación de vulnerabilidad

una solución como ve estamos trabajandodesde el departamento y se ha actuado dentro de las normas con la mayor flexibilidad y sensibilidad teniendo en cuenta el momento que atravesamos y las necesidades de vivienda que aprietan a miles de personas en euskadi

sino también con otro tipo de políticas como son las ayudas al pago del alquiler y decirle que la mitad de

gracias señora presidenta señor fernandez de betoño la decisión sobre la resolución del contrato del tramo miraconcha easo de la variante metropolitana del topo donostia ya se la anticipé dos semanas así como los motivos de esa medida

dado que además de que en esta obra se han aprobado ya anteriormente dos proyectos modificados

impiden legalmente por su naturaleza y por su coste modificar sobre la marcha el proyecto adjudicado ya que suponen una alteración de las condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación concretamente en este caso se darían como mínimo los supuestos contemplados en los epígrafes bi y e

alterar la relación inicial alterar la relación entre la prestación contratada y el precio

otros interesados o que los licitadores que concurrieron hubieron podido

en el contrato de este tramo por lo que ajustándose al espíritu y a la letra de la ley

y a licitar un proyecto reformado que recoja las intervenciones que se requieren para culminar las obras con la mayor seguridad

que efectivamente los ha habido los habrá

le reitero que los problemas geológicos hallados en dos puntos muy concretos en ese tramo

me ha referenciado algunos yo lo que le dije y le digo

se ha producido esta situación debido a circunstancias que se producen en proyectos complejos

el campo de intervención y es que no se conoce obra pública de envergadura que haya estado libre de incidencias máxime cuando discurre por el subsuelo de una trama urbana densamente consolidada hace dos semanas le recordé la paralización y rescisión del contrato de la obra

en dos mil quince se lo vuelvo a recordar estaba su grupo al frente de la diputación foral de gipuzkoa en aquel entonces y el motivo también fueron importantes sobrecostos

detectados en el trazado y esto que este discurría por un terreno abierto y no por el subsuelo de una ciudad como la de donostia san sebastián no sé si exigieron ustedes responsabilidades

a mí informe de responsabilidades qué ha pasado aquí queremos saber no sé ustedes si exigieron entonces responsabilidades pero no lo creo no lo creo sino que asumieron la situación hicieron frente al problema

una obra que era necesaria para gipuzkoa y usted siempre habla

y la variante del topo no es un proyecto solo para ir del antiguo a la concha

la variante del topo es una obra clave que se enmarca en un conjunto de actuaciones para dar servicio

para ofrecer un sistema de transporte moderno rápido sostenible y eficaz

y para que tengan una alternativa al uso del vehículo privado en sus desplazamientos para eso se hace un sistema que se reforzará
con el intercambiador de riberas de loyola y otras actuaciones que son fundamentales para conseguir ese objetivo gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak osasuneko

gracias presidenta buenos días señorías consejera consejero

es una muy clara hay que mejorar en salud hay que mejorar en salud después de las lecciones que hemos podido aprender todos autoridades ciudadano profesionales y en este caso pues es una prioridad es una prioridad la tenemos que ver reflejada además en las actuaciones ya primeras del gobierno tenemos que ver reflejada lógicamente en el desarrollo de las mismas

los presupuestos y nos la tienen que contar y no tienen que decir sobre todo y en este caso en concreto

en inquietudes y en necesidades de futuro de futuro inmediato inquietudes y necesidades sobre salud

en este caso la salud pública en este salto cualitativo de necesidades que los poderes públicos tienen que afrontar nosotros hemos conocido ha habido muchos foros y muchos debates

internos asociaciones un reciente foro también sobre salud

en el que participaron y han participado vuelvo a decir que se ha extendido en el ámbito

de reuniones de foros de conclusiones de ideas sobre lo que hay que hacer y hemos visto

junto con catedráticos o profesores universitarios juntamente con representantes de asociaciones

empresas biotecnológicas biomédicas especialistas en enfermería analistas en sistemas sanitarios

que se ha realizado en algunos foros muy concretos y muy importantes también supongo que lo habrán hecho también

y en todos estos foros fundamentalmente hay una serie de conclusiones vuelvo a decir en relación con la salud pública y conclusiones muy claras en relación además con las necesidades y con el futuro inmediato algunas de ellas tan claras como bueno que

ha puesto de manifiesto el papel clave de la salud pública la necesidad de esta disciplina

nosotros conocemos los programas de salud pública del gobierno vasco son programas

cantidad económica usted los conoce también la dirección la que tiene y

de salud pública tal y como estaban se ha demostrado

reforzar esos programas de salud pública y habrá que ver lo que se hace

que la inversión en salud pública ha quedado muchas veces relegada a un segundo plano

ya es una es una obligación también entre conclusiones interesantes que se ponen sobre la mesa se ha dicho que la pandemia ha provocado el covid diecinueve ha puesto en jaque

que ya de por sí se enfrentaba a importantes desafíos globales lo estaba haciendo en relación con la cronicidad con

se ha puesto sobre la mesa un problema más y por ello pues se entiende que se hace más necesario que nunca que los gobiernos

nacionales como los autonómicos incrementen la inversión pública con el objetivo de poner en marcha

prevenir esos riesgos además de proteger y promover la salud otra de las conclusiones se liga

de muchos de estos foros a la salud pública y a las vacunas pues se dice

se gestionará la compra entre otras cosas la distribución de la futura vacuna esperemos que llegue cuanto antes cuando esté disponible

europeo uniendo a los gobiernos con el objetivo de conseguir un precio justo y evitar problemas de suministro y abastecimiento también

del trabajo sobre la vacuna pues aquí tenemos empresas importantes biotecnológicas biomédicas

y desde luego es importante que se sintonicen y esos esfuerzos se concreten también por parte

interpelación aún no teníamos el programa de gobierno que hace un planteamiento de legislatura pero hoy se necesitan

actuaciones inmediatas de reforzar la salud pública y los programas presupuestarios y de actuación sanitaria inmediatas hemos visto que hay algunas iniciativas en el programa de gobierno uno y tres del capítulo once de salud de su programa de gobierno mejora la integración de salud pública y los servicios y la atención sanitaria y lo lógico

dentro de ese compromiso setenta y uno de reforzar la atención

el tema de la ley de salud pública bueno como no ha venido el programa de gobierno acompañado del calendario pues bueno la de salud pública igual la vemos en esta cámara dentro de dos años

que es necesario actuaciones de refuerzo de la salud pública ya efectivamente la ley de salud pública la debatiremos

y entenderemos cuáles son de todo lo que hemos aprendido las mejores claves para hacer

la salud pública pero son necesarias las actuaciones ya y es necesaria además

de superar las deficiencias en políticas de salud pública que se han identificado y que han sido

sido unas circunstancias desde luego impresionante tremenda ha afectado a

de los equipamientos de la protección física de la ciudadanía en unos determinados momentos muchas veces también de la información la información contradictoria

y tenemos que estar preparados y eso requiere ya el análisis

de más recursos y más actuaciones y por eso nuestra

del departamento de salud del gobierno vasco también hay presupuestos

el de salud pública significativo por la pequeña cantidad que tenía que ha tenido históricamente consignada

los programas de salud pública entre los que se encuentra la política y estrategia de vacunaciones

dentro de los capítulos de salud pública

y efectos de la pandemia del covid en nuestra sociedad ese es el tema

que se han demostrado y que los expertos consideran que son necesarios reforzar como prioritarios muchas gracias eskerrik asko

interpelación hace usted referencia señor barrio a dos cuestiones una muy genérica sobre cómo se van a reforzar los programas de salud

y otra muy concreta sobre cuál va a ser la política y estrategia de vacunación en el marco de esas políticas en este sentido

algunas cuestiones que no les serán desconocidas porque se han contado desde el departamento en más de una ocasión a iniciativa propia y a preguntas de esta cámara

destinados a reforzar los programas de salud pública empezando por estos últimos desde el inicio de la pandemia se han adoptado desde el departamento de salud

en relación con los hechos la primera ola de la pandemia por covid diecinueve en nuestra comunidad autónoma apareció el veintiocho de febrero de dos mil veinte además de la constitución de comités

y desde la perspectiva asistencial también se elaboraron planes de contingencias para la habilitación y despliegue de camas uci en función de cada escenario

se definió un plan de recursos humanos para reforzar las plantillas de las uci con personal médico y de enfermería procedente del conjunto de la red de osakidetza recolocando profesionales con experiencia

la formación y reciclajes específicos para incrementar el número de profesionales con competencia para trabajar en estas unidades en atención primaria se desarrolló una herramienta clave como han sido las consultas telefónicas tanto las de los médicos y las enfermeras con sus pacientes como las interconsultas entre

la crisis de la covid diecinueve ha estrechado la relación entre los y las profesionales de atención primaria y hospitalaria este es un valor que no debe perderse una vez superada la crisis emergencias el servicio de emergencias de osakidetza ha realizado dos labores cruciales en la crisis de la covid diecinueve pacientes infecciosos y atendiendo al teléfono del consejo sanitario que se convirtió en la referencia de la ciudadanía para consultas de sintomatología sobre la covid hemeretzi en el ámbito sociosanitario

apoyo a la contención de la covid diecinueve desde los laboratorios la realización de pruebas ha supuesto una mejora en la logística de recogida selectiva de muestras

para integrar los resultados en las historias clínicas y en los informes que eran necesarios para el departamento de salud

han venido acompañadas de medidas de reorganización del personal de aumento de plantilla y de actuaciones de formación y otra novedad que ha venido para quedarse es la creación de un stock estratégico de epi y materiales diversos de protección para los y las trabajadoras de salud

entre los propósitos estamos trabajando cuatro documentos que van a ser la guía del departamento en el fortalecimiento y ampliación de los programas de salud pública

ambos documentos que superan el marco temporal de esta legislatura el documento bizi berri de transición sanitaria social económica que ya conocen y finalmente el marco estratégico que estamos elaborando para el periodo

este documento aún está en construcción pero quiero adelantarles algunos de los objetivos que contemplamos algunos muy relacionados con la situación

actual por ejemplo conseguir rastreos de todos los positivos en veinticuatro horas a partir del diagnóstico

la ampliación de la colaboración interinstitucional e intersectorial porque la salud pública el bienestar trascienden de este departamento e interpela al conjunto de la sociedad y las instituciones

la pandemia ha revelado situaciones de desigualdad social entre colectivos por eso queremos dedicar una atención especial a colectivos vulnerables personas mayores personas con discapacidad personas del colectivo

personas migrantes creación de un observatorio de salud que nos ayudará a una mejor planificación y toma de decisiones y por supuesto

atención hospitalaria y atención primaria con una atención centrada en la persona y comprometiendo nuevas inversiones en infraestructuras equipamientos y personas

y ciñéndome al tema más concreto de las vacunaciones el departamento de salud

de la covid diecinueve en euskadi para adecuar los protocolos y medios de respuesta en coordinación con el resto de comunidades autónomas en relación a la futura vacunación frente al covid diecinueve poco podemos aportar en estos momentos

y las fechas en las que estarán disponibles así como la cantidad de dosis que podrán utilizarse inicialmente pero no le quepa ninguna duda que estamos

señora consejera supongo que en el segundo turno me ampliará información no me cabe ninguna duda en relación con las cuestiones que

durante todos estos años es un presupuesto es decir no sé cómo funcionará en este caso la distribución presupuestaria pero hasta ahora

cantidad la mayoría desde luego gastos de funcionamiento de la estructura

hoy resultarían irrisorias porque veíamos formación en

o por ejemplo tipado de enfermedades emergentes cinco mil euros dentro de un programa de salud pública

nosotros sí que entendemos que tiene que haber un esfuerzo y que ese esfuerzo se tiene que materializar en los recursos y nos gustaría saber cuál es esa previsión en relación con esos programas ya presupuestarios de acción directa ya en relación con la salud pública

que hay que reforzar todos esos programas como hemos dicho en la primera intervención es importante lo de la ley de salud pública se lo decía al principio que viene en el programa pero como no sabemos cuándo va a entrar que puede ser ya sabemos el proceso de elaboración de las leyes

hasta ese momento y fruto de la crisis sanitaria que todavía vivimos

adoptar una serie de medidas que ustedes tienen que de las que hablar y que anunciar y que tener ya

en el concepto general esa salud pública de actuación pública

la salud pública compete en buena medida a otras administraciones no digamos nada de los ayuntamientos

al esfuerzo de los profesionales desde luego esa es la ejemplaridad de este momento pero a esos profesionales

de una manera más decidida y eso sí que que nos ampliase y que cuáles son las previsiones y además eso reconocer que ha habido disfunciones que tenemos que superar esas disfunciones

ese presupuesto de salud pública y hacerlo de una manera clara hay una cuestión que sí que también entra dentro

de estas claves no en salud pública ahí funcionan y tienen que funcionar

los expertos los virólogos los epidemiólogos las previsiones en un momento como este también todavía de incertidumbre no en relación con el futuro no es decir hemos vivido y usted lo conocerá una situación pues lamentable en relación

el consejo asesor de enfermedades infecciosas no sustituido en plena pandemia por un comité

determinadas decisiones eso no funcionó bien eso

pues en estas cuestiones también tiene que haber reforzamiento tiene que haber programas supongo que estará trabajando usted sobre la base

asesores científicos sobre enfermedades de estas características que irrumpen de esta manera brutal en la sociedad

es importante eso también es reforzar esos comités asesores científicos médicos especialistas es reforzar los programas de salud pública y sí que nos gustaría pues saber qué planes tiene usted también

con personas expertas algo que ha funcionado muy débilmente en la crisis durante el periodo anterior a las elecciones entendemos que esas claves las claves de los expertos las claves del reforzamiento de los programas presupuestarios de salud pública las claves de la coordinación institucional en materias de salud pública son elementos desde luego que hay que reforzar

adquisición de la inmunización de la población

desde siempre y especialmente durante el desarrollo de esta pandemia para el refuerzo de las políticas de salud pública y contado con todas aquellas herramientas que ha considerado necesarias para poder gestionarlo de forma adecuada

entre instituciones es permanente en estos momentos de hecho se está trabajando en el seno del grupo técnico de la ponencia de vacunas de la comisión de salud pública

contemplando varios escenarios porque algo hemos aprendido y en eso estamos totalmente de acuerdo y es que no tenemos certeza sobre el desarrollo de la pandemia

y eso tiene que ser así y además de las que estén disponibles y de las indicaciones terapéuticas en función de la edad y grupos a los que finalmente

autorice su uso población infantil y adulta enfermos crónicos inmunodeprimidos embarazadas los grupos de mayor riesgo la unión europea

que actualmente se están desarrollando estas vacunas cuando estén disponibles se distribuirán entre los países miembros de la unión europea en función de los criterios de priorización que se establezcan en euskadi ya hemos la compra y preparación del material logístico adicional que también va a ser necesario para esa vacunación jeringuillas agujas distinto tipo de material complementario

que la vacunación en el momento de que tengamos la dosis sea una realidad esas concreciones tienen que esperar

campaña en la campaña de vacunación de la gripe en esta situación con una preocupante curva creciente

es crucial para evitar la saturación de los servicios y mantener en las

le puedo asegurar que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para poder dar protección a las personas que trabajan en servicios esenciales seguridad al conjunto

y por supuesto la colaboración entre las distintas instituciones a todos los niveles y nuestra participación

este grupo de trabajo integrado en el consejo interterritorial y formado por secretaría

y un representante de cada comunidad autónoma tiene el objetivo de definir las líneas de una evaluación

en definitiva establecer un marco que abarque el alcance los objetivos los parámetros y aquellos aspectos que sean el objetivo es sin duda fortalecer el sistema nacional de salud para afrontar con las máximas garantías los retos que tenemos en el futuro

crisis sanitaria como la que estamos padeciendo evaluación que permitirá sin duda también identificar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema nacional de salud y adoptar aquellas decisiones que puedan ser pertinentes y necesarias para

y el conjunto de la asistencia sanitaria le preguntamos señora consejera porque nos ha causado cierta sorpresa

de desmarcarse de este grupo de trabajo quizás las obsesiones de un gobierno recentralizadoras de un gobierno

cuyas conclusiones cuyas reflexiones seguro que serán beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía vasca parece ser que euskadi ha constituido su propio grupo de trabajo que puede estar muy bien

cree su propio grupo de trabajo pero señora consejera la creación de este grupo no puede servir de excusa para no participar de mayor escala en el que poder aportar nuestra experiencia nuestras aportaciones y beneficiarnos y tener información

realizando en otros lugares por lo tanto le preguntamos por qué ustedes han valorado quedarse al margen de un grupo de trabajo que sin duda nosotros consideramos que la participación de euskadi en dicho grupo puede redundar en beneficio de los ciudadanos vascos

presidente andrea legebiltzarkideok en la

interterritorial de fecha siete de octubre se propuso sí crear un grupo de trabajo específico para el diseño de una evaluación del sistema nacional de salud durante la pandemia

euskadi no aceptó participar en la evaluación propuesta por el ministerio porque contamos con un sistema sanitario propio y un servicio público vasco de salud

entendemos que es aquí en euskadi donde debemos realizar el análisis de la gestión de la pandemia más aún ya estamos explorando diferentes

pondríamos a disposición del gobierno español y así se lo hicimos saber al señor ministro

desde hace meses venimos observando un proceso de recentralización en la forma y en el fondo en las decisiones que se adoptan o proponen desde el ministerio ya lo manifestamos en mayo en las conferencias de presidentes en lo planteado como agencia nacional y recientemente

abogando por reforzar el sistema nacional consideramos que este es un paso más en esa dirección y por eso manteniendo una actitud de respeto a los acuerdos adoptados y la colaboración permanente con todas las instituciones

no participar eso sí y lo reitero poniendo a disposición lo que en virtud de nuestras competencias hagamos eskerrik asko eskerrik asko

y precisamente en el consejo interterritorial participa el estado y las comunidades autónomas efectivamente hay competencias sanitarias que están transferidas las competencias sanitarias y nosotros tenemos en ese sentido osakidetza el sistema vasco de salud como lo tienen otras comunidades autónomas y por qué participan otras comunidades autónomas

creo señora consejera que son excusas son excusas que además hacen que los vascos perdamos una oportunidad de beneficiarnos de las reflexiones y las conclusiones que salgan en un grupo de trabajo cuando estamos ante una pandemia que es un fenómeno global y que nos está afectando a todos

de países nos habla del proceso recentralizador yo creo que aquí

no le he oído ni a usted ni al lehendakari ni a ningún miembro del partido

decir nada no sé qué dirían si ustedes presentan las cifras de madrid qué puede pasar y se decreta el estado de alarma en

de sorpresa qué quiere que le diga porque si durante estas últimas semanas algo se ha visto en el consejo interterritorial ha sido

es el partido popular en la defensa de las competencias de salud allí donde tiene la responsabilidad de su gobierno

porque en el consejo del día treinta de septiembre el ministro de sanidad planteó una serie de criterios técnicos para aplicar en poblaciones de más de cien mil habitantes cuando se dieran una serie de circunstancias relacionadas con la incidencia de la covid o la disponibilidad de camas de pacientes en las

las medidas mayores restricciones en el movimiento de personas entradas y salidas de municipios reducción de aforos horarios más restrictivos

en primera instancia nosotros nos opusimos por qué porque no se mantuvieron las formas propias de un proceso de colaboración y porque no se había logrado un consenso técnico sobre su contenido

sin embargo finalmente votamos a favor sí por dos razones la primera porque acordamos

con el ministerio que esas medidas podían modularse en su aplicación en función de las circunstancias especiales de cada caso y siempre

volvemos a poner en duda de hecho en el propio consejo se introdujo la condición de documento abierto y vivo a revisar semanalmente por las comisiones técnicas y en segundo lugar

y en aquella votación hubo tres comunidades del pp que se opusieron a la aprobación de tales medidas lo que ha ocurrido de ahí en adelante lo que ha hecho cada comunidad en defensa de sus competencias es conocido y a mí no es a quien le compete pronunciarme al respecto yo le insisto tenemos un sistema de salud propio

está dando resultado y que creemos debemos ser sometidos a una evaluación

por eso queremos nuestra evaluación porque tenemos nuestro sistema eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera

señor arzuaga nosotros también compartimos esa preocupación y

pero que sepa también que nosotros tenemos esa información a través de los medios de comunicación como usted bien sabe no tenemos competencia de momento y esa información se nos traslada la conocemos de esa forma espetxe batean hiltzeak sufrimendu

una muerte en una prisión conlleva un sufrimiento añadido tanto para el entorno más cercano

me entristece y me preocupa como ciudadana y como gobierno

pero también me ocupa como responsable política de un gobierno que debía estar gestionando desde hace décadas las instituciones penitenciarias tal y como se recoge en el estatuto de gernika

un paso más en la construcción de euskadi y por primera vez la transferencia de la competencia para la organización régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios y de reinserción social aparece en la agenda política de un calendario pactado entre las representaciones y española marzo

y nuestro objetivo es poder mejorar y reforzar el carácter resocializador de las prisiones

desde una perspectiva rehabilitadora generará una sociedad mejor más integrada y más segura y confío señor arzuaga que en este objetivo común aunemos esfuerzos

muy lejana y no me refiero solamente a una cuestión de kilómetros sino porque es imposible interpelarle

exigirle detalles exigirle responsabilidades más aún para estas organizaciones sociales que trabajan con los presos

competencia lo va a facilitar porque la responsable va a ser usted va a estar más cercana espero que también esté más próxima a estos colectivos más abierta a estos colectivos y creo que va a tener que dar muchas explicaciones porque

de por qué se produce semejante mortandad en prisión en una prisión una prisión que hoy está en nuestro territorio y que dentro de poco va a ser responsabilidad de cómo se han desencadenado los hechos de si se han puesto en marcha las oportunas investigaciones y sobre todo qué va a hacer usted para prevenir

que nos adelante cómo pretende gestionar las prisiones porque nosotros sí que tenemos expectativas de que se pueda ejercer de otra manera esta competencia si es para ejercerla

décimos mejor no asumir esta competencia si tenemos esta atribución que sea para hacerlo de otra manera nosotros sí que hicimos los deberes

usted solicita aunar esfuerzos y lo haremos pero también querría saber cuáles son las expectativas o cuál va a ser la forma en la que vaya a enfrentar esta competencia

y que se está cobrando sus vidas creemos que esta sociedad tiene otra sensibilidad hacia las personas presas para hacer valer sus derechos tanto los derechos más básicos a la vida a la salud a la integridad física hasta el derecho más específico de la persona que es precisamente el recuperar esa libertad

entendemos que hay que abordar una larguísima tarea una lista de acciones de

desde la colaboración como no puede ser de otra forma para nosotros el trabajo realizado en el parlamento vasco para profundizar y avanzar en el diseño de un modelo penitenciario vasco

en ese documento se trabajó de una forma intensa se abordaron una serie de cuestiones se acordaron esas cuestiones y ese va a ser uno de los elementos fundamentales para poder

que se abordó el trece de marzo en el año dos mil diecinueve en esta cámara y que se consensuaron dichas resoluciones y esas resoluciones fueron integradas en un documento que hemos trabajado ya en el gobierno bajo el liderazgo del anterior equipo de la consejera san josé

me gustaría destacar que vamos a trabajar por un modelo penitenciario que ponga el acento en la reinserción social que impulse las prácticas restaurativas y el acceso a los derechos sociales un modelo más humanizado y respetuoso con los derechos humanos

la primera potenciar las penas y medidas en medio abierto que son menos dañosas que evitan los efectos perjudiciales del encarcelamiento y que son más eficaces y eficientes

una red que realice una atención individualizada e intensiva y en tercer lugar orientar el internamiento penitenciario a la reinserción y esos van a ser

eguerdi on guztioi artolazabal sailburua eguerdi on hoy venimos con un tema que consideramos

y la exclusión social y el veinticuatro de octubre se celebra el día de las personas sin hogar estos días nos sirven de recordatorio de que en nuestra sociedad hay cosas que no funcionan normal como es el hecho de que haya personas que no tienen un techo bajo el que dormir y además con el confinamiento se ha puesto de manifiesto la terrible situación y la paradoja de quédate en casa para quienes no tienen casa

así como de las que se encontraban en los diferentes centros y servicios habilitados

estas personas el número de personas se había doblado en los dos últimos años es decir en euskadi

y además el nivel de ocupación de los centros rozaba el ochenta por ciento con la pandemia y a tenor de los datos actualizados que ofrecen los informes de las organizaciones del tercer sector

que culmina este año señora artolazabal queremos saber cuál es el nivel de cumplimiento a día de hoy y cómo se han adaptado las directrices previstas de dicha estrategia

de este parlamento en las políticas dirigidas hacia los colectivos más desfavorecidos la estrategia vasca

un instrumento adecuado para mejorar el sistema de atención al sinhogarismo prevención e intervención temprana con el objetivo de conseguir una reducción del número de personas sin hogar esta estrategia finaliza en el año veintiuno y este colectivo

recursos dirigidos a todos el recuento anual como usted dice es una estimación los datos del dieciséis daban unas cifras que se incrementaron en el año dos mil dieciocho

el informe de seguimiento de esta estrategia ya fue remitido al parlamento el año pasado así que está

y este informe constituye un balance de las actuaciones realizadas durante el año dieciocho por todas las entidades adheridas a dicha estrategia y como sabe esta iniciativa tiene un carácter interinstitucional y es orientador y voluntario

importante actuar y prestar atención a las mujeres en exclusión residencial que siendo un porcentaje menor respecto a los hombres sufren una mayor vulnerabilidad y la estrategia cuenta con un eje específico que refuerza la perspectiva porque este colectivo es muy heterogéneo y muy complejo

habían tenido ya un desarrollo satisfactorio con una puntuación superior

cero tres aquí tengo más o menos un gráfico en el que podemos ver que el desarrollo del enfoque basado en la vivienda ha alcanzado una puntuación de dos coma siete

la mejora de los recursos y programas un dos coma uno la garantía de acceso a los derechos mediante regulación administrativa dos sobre tres pero eso no significa que todo esté bien hecho tenemos muchos retos por delante

trabajando le aseguro además que las instituciones vascas de la mano del tercer sector social hemos sabido responder con eficacia al agravamiento del sinhogarismo provocado por esta pandemia

eskerrik asko azalpenengatik bueno sin embargo permítame artolazabal que sigamos mostrando nuestra preocupación con algunas cuestiones en su momento ya le transmitimos los temores que teníamos porque se presentó la estrategia pero no se ve el tema de la voluntariedad de la participación en ella

y presupuestos sobre todo que eso se traduce

hemos tenido muchas dificultades para encontrar datos concretos a través de las páginas oficiales de cómo va la estrategia no hemos encontrado planes concretos ni estudios concretos que se hayan publicado recientemente los únicos

que de la aplicación de la estrategia y bueno pues cuando actuamos con urgencia pues a veces el cambio hacia otro modelo

no es todo lo eficaz que deberíamos bueno un poco de lo que hemos visto es lo no hecho en materia de mencionaba la transversalización de género

que se haya visto además ahora siendo usted consejera también de igualdad

un foco que tenemos que poner claramente sabemos que las mujeres se enfrentan a mayor peligro en las calles que tienen

agresiones sexuales que las mujeres además sufren el sinhogarismo encubierto

alargan la convivencia con personas de su entorno para evitar situaciones

porque vemos pocos esfuerzos en incorporar a las actuaciones institucionales nuevos enfoques para erradicar el problema del sinhogarismo y no

y por acabar bueno pues nos preocupa que hayan dejado también pasar la oportunidad de incluir proyectos financiables a través de los fondos europeos para el tema del sinhogarismo cuando en europa

y bueno y que yo creo que es una oportunidad desaprovechada en euskadi de tener una nueva herramienta

se ha gestionado y se ha realizado con la participación de muchos agentes no solamente de las instituciones sino también de muchos agentes sociales

de cara a evitar o a reducir esta situación en el ámbito de la igualdad comparto lo que usted dice las mujeres son víctimas más vulnerables todavía

y por eso es por lo que se puso dentro de esa estrategia un eje específico para este colectivo de mujeres

o todas las iniciativas que a nivel europeo se puedan presentar no está cerrado tenemos plazo hasta marzo del año dos mil veintiuno y estamos trabajando en muchos serie de proyectos como tenemos que hacer yo sí que creo señora

que hemos sido capaces de abordar con diferentes proyectos que no solamente estamos enfocados a que o tenemos esa visión de hacer una situación para que la gente que vive en calle no viva en calles sino que tenemos también

un itinerario para que estas personas puedan alcanzar

mejor estándar de bienestar para eso hemos puesto en marcha programas como el de lehen urratsak como el de aterpeak en el que esas personas en un momento tuvieron un alojamiento y ahora estamos también intentando

sailburuari gaur da gure lehenengo buruz burukoa es la primera vez que tenemos la oportunidad de discutir cara a cara

momento como el séptimo de caballería cuando ya pensaba que iba a tener que hacer un monólogo porque no le veía en la cámara pues también le voy a saludar con una frase cinematográfica diciendo que espero este sea el comienzo de una gran amistad interpelazio

le voy a enseñar un titular de prensa bares y comercios cierran ante la inacción

es un titular que hace referencia al pasado concretamente al trece de marzo de dos mil veinte unas fechas que creo que nos han quedado grabadas en la memoria colectiva porque fue una especie de inicio de todo esto que no termina de terminar valga la redundancia es un titular por tanto que hace referencia al pasado a marzo de dos mil veinte

bares y comercios cierran están cerrando ante la inacción del gobierno vasco

bares y comercios van a cerrar seguirán cerrando cerrarán en el futuro ante la inacción del gobierno vasco y eso es lo que queremos tratar tratar de evitar que esa inacción que hasta ahora ha sido manifiesta se prolongue en el futuro que se dé de una vez por todas un punto de inflexión y que el gobierno vasco asuma la realidad de la enorme difícil de exagerar gravedad de la situación que está pasando el sector del comercio la hostelería y el turismo en nuestro país

la hostelería y van a ser los últimos están siendo los últimos en recuperar la normalidad tal es así que todavía ni la han recuperado

decimos que el gobierno no ha respondido y el gobierno no ha estado a la altura

en estos momentos pero creo que tenemos que saber de dónde venimos qué tipo de políticas se han implementado qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho para articular poder articular

de rumbo en las políticas públicas por parte del gobierno central ha habido dos medidas que han dado cobertura al sector o los sectores de los que estamos hablando fundamentalmente compuestos

autónomos y por otros que han entrado en situación de erte en ese sentido ha habido una cobertura

ante la crisis ha sido bienintencionada ha ido en la buena dirección aunque luego se ha quedado corta y no ha estado bien desarrollada pero que conste aquí que por nuestra parte efectivamente tanto el sistema de erte que se ha articulado para dar respuesta a la crisis como el del cese de actividad de los autónomos han permitido generar una mínima de seguridad pero evidentemente no estamos hoy hablando aquí de la intervención del gobierno central sino del gobierno del que usted forma parte aunque no formara parte en el momento en que se desató

realmente trágica creo que tenemos que recapitular como decía antes lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho y ha habido

por un lado unas ciertas moratorias retrasos y también

al sector de los autónomos con una gestión que creo que deja bastante desear y ahogando en la burocracia a estos sectores ha habido unos bonos que han tardado

autonomoen laguntzen inguruan es que no me quiero recrear en los errores en la gestión en los colapsos de las páginas web en la carrera etcétera recientemente hemos conocido que las ayudas que se

se agotaron once horas y quince minutos después eso significa que efectivamente ha habido una carrera otras ayudas se han sorteado pero lo que no ha habido es una lógica de dar derechos y dar cobertura

su gobierno ha dejado fuera a la gran mayoría del colectivo damnificado porque no ha generado una ayuda universal que diera cobertura a todas las personas

de las circunstancias o de las condiciones requeridas sino que bueno ha hecho esta carrera en la cual se ha premiado a las seis mil primeras afortunadas porque también tenemos en respuesta a una pregunta de nuestro grupo los datos

un cuarenta por ciento de las personas que solicitaron las ayudas que entraron en plazo además

por las trabas burocráticas de las dificultades de la propia solicitud pues solo un cuarenta por ciento de esas personas han recibido esas ayudas por tanto no es extraño que un colectivo de autónomos nos cite o nos parafrasee aquello de mateo

muchos los perjudicados pero pocos los elegidos esta es la sensación

entre el comercio entre la hostelería muchos los perjudicados y poco los elegidos

reducción de ingresos requieren que el setenta y cinco por ciento de los ingresos

lo que significa que las condiciones son prácticamente imposibles porque cualquier sector mucho antes de llegar al setenta y cinco por ciento de pérdidas no es que pidan las ayudas por cese sino que realmente entiende que su negocio no tiene futuro

eguerdi on guztioi si me permite señor casanova voy a empezar corrigiéndole creo que la cita correcta no es una gran amistad sino una hermosa amistad

una relación leal y constructiva bueno como ya le dije en el anterior pleno de control y lo vuelvo a repetir cuantas veces haga falta para mí como consejera y como socialista mi prioridad son las personas su salud sus empleos y su situación económica

contamos con un plan estructurado multidisciplinar y coordinado con el resto de instituciones involucradas

partimos efectivamente de una situación realmente difícil y no hay que poner paños calientes y somos muy claros y yo desde que he llegado lo estoy siendo de las ciento noventa y dos mil personas trabajadoras que han estado afectadas por erte en nuestra comunidad autónoma un cuarenta y cuatro coma siete

correspondían a los sectores por los que ustedes hoy me interpelan el veintiuno coma nueve de los afiliados del sector del comercio

y especialmente afectado ha sido el sector de la hostelería con un sesenta y cinco por ciento de personal en erte más de treinta y siete mil personas situación realmente crítica

la caída de ventas en la hostelería se sitúa en un sesenta y cuatro coma tres en el segundo trimestre de este año

este diagnóstico por lo tanto es una situación dura y aunque el número de erte ha disminuido

una situación que requiere la implicación de las diferentes administraciones de los agentes sociales y también la cooperación de todas las fuerzas políticas por mi parte van a tener la mano tendida para esta cooperación y un ejemplo de esa cooperación necesaria la encontramos en la medida que es fundamental usted la ha mencionado que para aguantar en esta fase y poder remontar lo más rápidamente posible cuando remita la pandemia

y hasta finales de enero ha sido posible gracias a la concertación social entre el gobierno de españa y los agentes sociales

igualmente y quiero destacar que casi la mitad de los beneficiarios de este complemento corresponde a las personas afectadas

nuestra estrategia se basa básicamente en dos tiempos una primera fase de resistencia cuyo objetivo primordial es ayudar a las empresas y autónomos a resistir

en el mantenimiento de los empleos y una segunda fase de reactivación

fases que parten de una consulta y análisis con el sector que seguiremos realizando de continuo

llevo toda la mañana reunido con el sector de la hostelería con el que ya me reuní pero hoy hemos tenido una reunión con los tres presidentes y los tres secretarios generales de las asociaciones de hostelería y hemos estado toda la mañana reunidos

surgió el programa de ayudas extraordinarias covid diecinueve dotado de quince millónes de euros

del presupuesto que maneja este departamento con lo cual yo creo que no es desdeñable una cantidad de quince millónes de euros este programa viene a completar las ayudas habituales del departamento que ya se ha reorientado a las necesidades de la crisis del covid y con este programa vamos a ayudar a cinco mil cuatrocientos empresas turísticas y hosteleras y establecimientos comerciales dos mil ochocientos comercios

debemos tener en cuenta que en euskadi el sector del turismo y el comercio se compone por una mayoría de microempresas y personas autónomas

y que da empleo a doscientos treinta mil personas a estas empresas

en el caso de los autónomos se suman los otros quince millónes de lanbide de los cuales el sesenta por ciento también está destinado a nuestro departamento al sector del comercio turismo y hostelería y desdeña usted señoría la puesta en marcha de los bonos euskadi turismo bono y euskadi bonodendak diciendo que llegan tarde bueno pues creemos que es una herramienta eficaz

de la crisis y contribuir a activar el consumo de las familias que también se ha visto limitado se trata de una iniciativa pionera

consenso institucional es decir las siete instituciones y eudel unidas en una estrategia común y pionera

anteriormente este tipo de bonos son nueve millónes de euros cinco coma siete millónes aportados por el departamento

una vez que finalice la analizaremos y estudiaremos junto al sector al igual que

hablamos por lo tanto de ingresos para turismo hostelería y comercio y capacidad de gasto añadida para las personas que también están padeciendo esta crisis

en estos sectores y teniendo en cuenta además el ámbito comarcal y local que será especialmente favorecido por la iniciativa y afirmar que llegan tarde bueno debo decirle que fue el propio sector el que nos solicitó que estos bonos se destinasen en esta época no en la época estival

que ha sido escuchando y atendiendo la iniciativa del sector por lo tanto ante una situación difícil como es la que está pasando el turismo la hostelería y el comercio de euskadi estamos actuando

para afrontar con éxito los retos que teníamos pendientes y los que surgirán después

para eso contamos con un programa de gobierno dos mil dos mil veinticuatro para esta doce legislatura euskadi en marcha del que bueno usted ya ha mencionado le daré cuenta más precisa en mi comparecencia de líneas generales y estratégica del departamento de turismo comercio y consumo

entrar en profundidad vamos a trabajar para adaptar el turismo a los nuevos modelos a los cambios que se manifiestan

buscando un turismo sostenible y responsable que incorpore los objetivos de desarrollo sostenible a su crecimiento nos proponemos como objetivo aprobar una estrategia vasca de turismo sostenible dos mil veinte dos mil treinta y vamos a dotarnos de un plan integral de turismo hostelería y comercio que aborde los aspectos desde un modelo de turismo de excelencia hasta los sistemas de gestión y la propia competitividad del sector

para la cohesión social el pequeño comercio de proximidad y la hostelería local van a ser nuestros referentes de actuación por ello les ayudaremos a afrontar los retos de futuro como son mejorar la competitividad la adaptación a la transformación digital y la formación de las y los profesionales

por la defensa de las personas consumidoras y su información y formación la promoción del consumo responsable y la sensibilización del consumo local

y en ello centraremos nuestra tarea de concienciación estas son las medidas que están dentro del plan de resistencia

compartimos parte del diagnóstico y seguiremos trabajando y espero que el día veintiocho en solo doce días podamos tener una comparecencia constructiva

más soluciones y más ideas programáticas para este futuro incierto y difícil que nos toca afrontar muchas gracias eskerrik asko hurtado jauna

egun on berriro no se tome a mal mi alusión a su tardía llegada yo soy plenamente consciente que cuando aquí no está un consejero es porque está trabajando en otro sitio y que las agendas son las que son simplemente

me ha dado varias claves y estoy absolutamente mucho más preocupado después de escucharle que anteriormente yo ya lo siento porque

prejuicios en el sentido de pensar de antemano venía abierto a la posibilidad de que me sorprendiera

a mi entender me ha emplazado para el veintiocho de noviembre

y qué pasa si mañana se decreta el cierre de la hostelería qué ayudas va a activar el gobierno mañana si

se van a quedar colgados de la brocha como les dejaron colgados de la brocha en el anterior cierre

como decía antes que no critico su orientación la de los ceses de actividad autónoma pero que son absolutamente insuficientes que pueden ser de seiscientos euros cuando la situación no es igual en estos momentos para la hostelería que la que era en marzo la situación es muchísimo peor porque acumulan un castigo

a nivel físico a nivel psicológico y a nivel económico y por tanto tiene que estar prevista una respuesta en un plan estratégico dos mil

lo que tenemos es que tener previstas medidas para tomar mañana no mañana ayer había que haberlas tomado porque a pesar de que ahora parece que hay un repunte que puede llevar a un cierre

la hostelería con las actuales medidas de restricción sanitarias no tiene capacidad por sí misma para subsistir en términos económicos

por las restricciones sanitarias dónde está la respuesta del gobierno vasco

cuando empiecen a no poderse utilizar las terrazas cuando los bares pequeños no puedan funcionar cuál es la alternativa que les va a dar su gobierno el plan estratégico dos mil treinta

de padecimiento absoluto y no quiero hacer lo que una compañera llama porno miseria pero es que la gente está sufriendo muchísimo

en amplias ramas del comercio otras tienen una mejor situación yo repito lo que dije en un medio de comunicación si los miembros de este gobierno incluso si los miembros de esta cámara

igual que las personas que están en el mundo del comercio y la hostelería las medidas se hubieran tomado hace mucho tiempo y me duele decir esto pero es así no hubiéramos aguantado esa situación y teniendo la potestad que tenemos para tomar medidas las hubiéramos tomado

eta que se pude decir mucho o se puede decir que es poco sí sí evidentemente

gutxi ez oso gutxi dela oso gutxi dela proportzioan daukagun egoerarekin es escandalosamente poco y las pruebas son que precisamente miles y miles de personas han quedado fuera de cualquier tipo de ayudas eta hori da arazoa zuek jarraitzen duzuela pentsatzen laguntzen terminoetan

egin duzuena zuek erabaki duzue gehiago ez egitea su gobierno tiene capacidad política jurídica y presupuestaria para hacer más

para generar un sistema de prestaciones y de derechos para estas personas y tiene la obligación moral de hacerlo de forma inmediata porque el problema está sucediendo ya y se va a agudizar en el futuro por tanto hablaremos de estrategias de turismo sostenible de calidad en el empleo hablaremos de eso

que este gobierno se centre en dar una respuesta inmediata y repito ha elegido no hacerlo

hablaba el otro día el consejero de keinesianismo cuando luego a la hora de la verdad aplica el liberalismo más estricto
tienen recursos para hacerlo por favor háganlo eskerrik asko casanova jauna amaitu da denbora hurtado jauna zurea da hitza

nada mal su comentario y decirle que

voy a contestar hablando de tres ámbitos uno del diagnóstico de las medidas y del futuro

y usted me ha escuchado a mí yo creo que compartimos gran parte del diagnóstico la dificultad es real yo estoy reunido con el sector desde el primer día que llegué

somos conocedores y las dificultades que usted plantea las estoy planteando yo con lo cual yo creo que tenemos un punto de inicio

de la dificultad que tiene la situación que podamos compartir usted ha mencionado el informe de orkrestra yo les facilitaré el día de la comparecencia digo que me remito a la comparecencia por del tiempo en esta interpelación hay muchas cosas de las que no podemos llegar

que me llegan se los voy a hacer llegar a ustedes en la comisión y los podemos compartir por ese lado

puede ser positivo si hacemos una buena evaluación del diagnóstico

usted no lo valora de la misma manera yo sí que valoro enormemente el acuerdo de lo erte

de las ayudas de lanbide que el sesenta por ciento van a autónomos que son de nuestro sector

de medidas extraordinarias le vuelvo a insistir usted conoce perfectamente el presupuesto y

este gobierno en las ayudas que tendrán que seguir por supuesto y tendremos que analizar

al tercer punto el futuro es que lo que tenemos es una incertidumbre y eso no lo digo yo lo dice el propio sector ellos lo que más les afecta es que no son capaces de poder calcular su punto de no retorno si tuviesemos la capacidad de decirle oye esta crisis va a durar seis meses nueve

composición de lugar y llegar pero es que eso no existe y eso no lo va a cambiar usted ni lo voy a cambiar yo es una pandemia mundial que vivimos con una incertidumbre y los datos evolucionan cambia la situación claro que estamos pendientes de lo que ha hecho cataluña de lo que

en pleno contacto con el sector ahora usted habla de medidas más dinero más prestaciones bueno concrételas bueno pues vamos a ver lo que vamos a ir trabajando y por eso le digo que hoy

yo le emplazo a por el próximo veintiocho hablar y

medidas que se tengan que implementar ahora dentro de la fase de resistencia

y según evolucione la situación tendremos que tomar otras nuevas y también tendremos que evaluar las que estamos tomando yo se lo he dicho soy defensor de la evaluación de políticas públicas usted ahora ya ha entrado pero ya le digo el bono

y ha sido demanda por el sector en las fechas que ha demandado el sector no como usted dice bueno y cuando acabe tendremos que evaluar y ver si ha sido beneficioso no ha sido beneficioso en qué podemos mejorar y ese es el cambio continuo ahora quiere usted que traiga yo aquí en una interpelación de diez minutos todas las medidas que vamos a tomar no pues vamos a hacer con ese trabajo riguroso

agradecerle el tono de la intervención y yo creo que

de trabajar y le emplazo a dentro de doce días en esa

a propuestas más concretas pues las evaluaremos igual que evaluamos todas las que nos plantea el sector

con el sector que lo está pasando mal y yo usted me seguirá entiendo que es un trabajo desde que he llegado en todas mis declaraciones públicas en todas mis intervenciones todo lo que he hablado con ellos usted también tiene relación con el sector sabrá lo que yo les estoy diciendo y lo que les estoy transmitiendo pues

y nosotros vamos a trabajar y vamos a redoblar esfuerzos para revertir esta situación sabiendo de la dificultad
para ello cuento con su grupo y todos los de la cámara muchas gracias eskerrik asko hurtado jauna